y cuál es la conclusión que hemos tenido que usar esa reserva en más de una ocasión que otras comunidades que confiaron en un abastecimiento regular

la planificación es acertada más allá de esa reserva

todo lo que llega porque tiene capacidad para ello esa planificación además prevé la colaboración de otros agentes con competencias en salud laboral como son los servicios de prevención y mutuas prevé la utilización de espacios más grandes y accesibles que las propias

cuando el volumen de vacunación lo requiere prevé incluso la vacunación a domicilio para los más vulnerables fruto de esa planificación también hemos decidido ampliar los puntos de vacunación en osakidetza

es complejo llevamos varios días trabajando en la posibilidad de habilitar más puntos de vacunación según lo previsto y podemos anunciarles

actuales a ciento diecisiete nuevos puntos de vacunación hogeita bostetik

para ser vacunadas y son personas de más de ochenta y noventa años y están esperando

al menos un calendario aproximado personas que han traído este país hasta este lugar solo le voy a decir una cosa sobre las muchas que le podría decir del proceso de vacunación vacunen más

nos acaba de explicar cuál es la estrategia yo puedo entender que se puedan guardar algunas dosis para asegurar esa segunda dosis para todas las personas

ciento diez mil vacunas guardadas casi el cincuenta por ciento de las disponibles a qué estamos esperando

se lo dicen los científicos se lo dicen los empresarios todo el mundo se lo dice y entiendo

se tendrán que guardar algunas dosis pero es que ciento diez mil vacunas es una cosa que no puedo explicarme

ustedes han aprobado los presupuestos generales del estado y aquí enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos

crítica al gobierno por el programa euskadi next en madrid aval al ingreso mínimo vital

me reuní con usted hace cuatro meses esperando un cambio de actitud nos vamos a volver a reunir dentro de dos semanas sigo esperando un cambio de actitud en positivo

en dos mil quince esta misma cámara aprobó la ley de vivienda impulsada por los socialistas vascos un hito para la historia de este país que desde luego

dándole sin duda un carácter infinitamente más social

ha anunciado recientemente que va a iniciar el proceso de elaboración del plan director de vivienda dos mil veintiuno dos mil veintitrés estos planes recogen

las directrices los programas los compromisos de las políticas de vivienda en euskadi y son herramientas fundamentales para avanzar en el desarrollo de esa ley de vivienda

y que hoy está dirigida y que hoy de alguna manera da el rumbo a esas políticas el departamento que usted lidera señor arriola el anterior plan director de vivienda el de dos mil dieciocho dos mil veinte incorporó por primera vez en su enfoque espíritu de esa ley el objetivo era claro era garantizar la función social de la vivienda y el derecho subjetivo de la ciudadanía a tener

supuso en primer lugar un impulso inequívoco a las políticas

de políticas públicas destinadas al alquiler son un hecho significativo en este sentido el desarrollo de alojamientos dotacionales la movilización de viviendas privadas vacías

protegido en segundo lugar ese plan director ha propiciado políticas dirigidas a una gestión más eficiente del parque de viviendas protegidas dando una vertiente social y sobre todo poniendo alokabide como un absoluto referente en tercer lugar

y acceso a la vivienda protegida en cuarto lugar ha apostado por la rehabilitación por la accesibilidad por la eficiencia energética por unas viviendas

un impulso a las políticas para la regeneración de los barrios más degradados en quinto lugar ha supuesto también

de otros modelos que se adecuen a las necesidades de la población especialmente en políticas dirigidas a los jóvenes con el programa gaztelagun que les da la oportunidad de emanciparse y sin duda

su proyecto de vida o impulsando también viviendas amigables en lo que supone una nueva estrategia para dar una oportunidad al

y a las personas mayores en sexto lugar ha reforzado la colaboración entre agentes institucionales en la colaboración institucional también está parte de la clave del éxito de las políticas de vivienda a través precisamente de políticas

de este plan director de vivienda el grupo de los socialistas vascos quiere preguntarle de cara a la próxima redacción

realizado desde su departamento una evaluación de los resultados del plan director de vivienda relativo al periodo de dos mil dieciocho al dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor andueza aunque apenas han transcurrido dos meses

ya disponemos de un avance de los resultados del plan director que ha guiado las políticas de vivienda de euskadi en los últimos tres años

y que puso en marcha el derecho subjetivo a la vivienda no le voy a negar que el escenario pandémico que vivimos ha condicionado los resultados obtenidos en determinado parámetros durante el último año pero esto no ha impedido en términos generales

del plan director atendiendo a los indicadores en materia de alquiler tanto el departamento como visesa han alcanzado el objetivo previsto a pesar de la incidencia de la suspensión temporal de las obras durante el confinamiento el departamento ha alcanzado el noventa y siete por ciento de sus objetivos

alcanzando el ciento dos por ciento entre ambos han puesto en marcha en estos tres años casi dos mil nuevas viviendas

hay que decir sin embargo que el objetivo global de viviendas de nueva promoción en régimen de alquiler

no ha alcanzado un nivel de excelencia por el bajo nivel de cumplimiento de la iniciativa privada y de los entes locales estamos ya trabajando para cambiar esta situación y favorecer su mayor implicación en un futuro inmediato con instrumentos como el decreto de habitabilidad o la actualización de precios públicos el programa bizigune por su parte con seis mil cuatrocientos cincuenta y uno viviendas vacías captadas para el mercado de alquiler protegido

al igual que las ayudas a los hogares más vulnerables a través de la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda

además en este tiempo hemos reconocido el derecho subjetivo a la vivienda a un total de seis mil ciento treinta y siete hogares un indicador que ha logrado

al noventa por ciento en materia de rehabilitación es donde la covid ha tenido una mayor incidencia en dos mil veinte sin embargo

elevados en concreto el programa destinado a particulares y comunidades de propietarios ha contribuido a la rehabilitación

un noventa y tres por ciento sobre el objetivo previsto pero quizás el dato más relevante que nos aporta el plan director es

de veinticinco mil ochocientos veintitrés viviendas una cifra que supera ampliamente

nos sitúa en una cuota del treinta y cuatro por ciento sobre el total del parque protegido sabemos que solo con un parque

a las necesidades de vivienda de la ciudadanía pero también que esto únicamente se puede conseguir a través del esfuerzo y el trabajo sostenido

es lo que estamos haciendo desde el departamento de planificación territorial vivienda y transportes y es lo que explica

desde dos mil catorce a septiembre de dos mil veinte euskadi se encuentre en segunda posición

tan solo superada por la comunidad de madrid que nos triplica en población con dos mil setecientos cincuenta y ocho estos son los datos

trabajadores a los que la empresa tubacex pretende despedir pero la verdad es que no es cierto no son ciento cincuenta trabajadores quienes viven una situación dramática son

con ellos toda una comarca y con ellos miles de trabajadores de diferentes rincones de euskadi que han mostrado su solidaridad la decisión que la empresa pretende ejecutar es innecesaria para la viabilidad de tubacex una empresa que además ha recibido y se sigue beneficiando también de dinero público en diferentes formatos

es una decisión absolutamente injusta y así creemos que debe decirse con todas sus letras lehendakariari entzun nahiko nioke erabaki injustua dela esanez

baztertzen dituela me gustaría escucharle decir que son despidos injustos y rechazar categóricamente estos injustos porque es una decisión que va a caer como un jarro de agua fría en una de las comarcas vascas más castigadas por el desempleo y esto es algo que lo convierte en un problema de carácter general

qué van a hacer ustedes para evitar estos despidos eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor hernández estamos actuando ante un sector que conviene situar en su contexto porque

está sufriendo una ralentización desde la crisis de dos mil ocho esta situación se ha visto agravada por otros motivos política de aranceles de trump competencia agresiva de asia o turquía o parada de proyectos

dada la reducción del uso del petróleo y el papel como energía de transición del gas natural dos recursos de los que depende tubacex de manera directa y que ustedes

del pasado año tampoco ayudaron y el gobierno vasco desde el primer momento ha puesto en marcha todo tipo de acciones para proteger la actividad y el empleo fondo covid

lehendakari jauna a su gobierno le suele faltar iniciativa cuando se trata de defender puestos de trabajo en riesgo por decisiones injustas gobernu hau

enpresak eta zuzendaritzak ez molestatzeko esta empresa no tiene problemas de viabilidad no tiene ningún problema de continuidad si no recurre a esos ciento cincuenta despidos

le viene bien económicamente despedir trabajadores que es muy diferente lo que se pretende es aprovechar la pandemia para destruir empleos de cierta calidad que puedan ser sustituidos en el futuro más baratos para la empresa y por lo tanto empleos más precarios ya sea aquí o en otro lugar por eso pensamos que el gobierno se tiene que oponer a estos despidos con rotundidad porque además de injustos de ser una pesadilla para ciento cincuenta familias de ser una desgracia para la comarca

a más de ocho millónes de euros recibidos en ayuda por parte de sus gobiernos a los directivos y propietarios de esta empresa hay que recordarles que la empresa nació en euskadi

de los obreros que ahora pretenden dejar en la calle tubacex ha tenido beneficios millónarios hasta entrado

mantiene un remanente de caja de más de ciento setenta millónes de euros

en foros empresariales y ante accionistas de las buenas previsiones plazo el grupo tubacex ha comprado recientemente varias empresas y lo ha hecho además en parte con prestamos públicos del ico en este caso acaba de llegar apenas un año a acuerdos con aliados saudíes para expandirse por oriente medio y a la vez pretenden vendernos que les es necesario despedir a ciento cincuenta trabajadores en euskadi

esto no es creíble pensamos que el objetivo de la empresa desde un principio fue reducir gastos de personal para incrementar o mantener beneficios a repartir entre sus accionistas

y pensamos que el gobierno debería defender a las y los trabajadores de este país el devenir global de la empresa

en euskadi y por eso pensamos que el gobierno vasco debería implicar con contundencia

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor hernández su intervención y su pregunta me suscita una interrogante y es la defensa de los puestos de trabajo sí la defensa de los trabajadores sí pero es curioso que se haga en relación a una empresa

que ustedes cuestionan permanentemente en todo caso el gobierno estamos actuando el mes de julio de dos mil veinte

a la situación de tubacex esta cuestión se ha analizado en el seno del gobierno y en las mesas compartidas con el resto de instituciones públicas agentes económicos y sociales

así como en la mesa de diálogo social estos últimos meses hemos seguido realizando todo tipo de acciones

dirigidos a ayudar a las empresas con una dotación de cuatrocientos treinta millónes de euros estamos actuando desde hace tiempo

y la atención del gobierno vasco con tubacex particularmente con tubacex hasta el punto de que la consejera visitó la sede de la empresa en austria

la semana pasada la consejera ha seguido manteniendo una relación directa con la dirección y con la representación sindical de tubacex se ha planteado una vía de diálogo

la pérdida de empleo es la peor noticia y por eso ambas partes deben explorar las vías para minimizar las salidas traumáticas a través de recolocaciones prejubilaciones excedencias o salidas incentivadas poniendo el foco en el medio o el largo participamos también

un proyecto para profundizar en la transición energética y en la actividad con potencial en energías emergentes como la eólica o el compromiso del gobierno vasco

para tratar de superar la situación proteger el máximo de puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades de empleo esta es nuestra prioridad eskerrik asko

así que desde mi grupo vamos a intentar y plantearle una ciaboga que quizá sea positiva porque otras no lo han sido hasta ahora mire usted hace pocas semanas nos anunciaban

ese conejo de la txapela pasan los días y de esa famosa ley no hay ni borrador de hecho ya sabemos que no aportará grandes novedades que prevalece el estado de alarma

es urgente su tramitación o sea venden humo donde usted dijo arre el primer informe jurídico les ha dicho so lo mismo sucede con la vacunación aquí en euskadi desorientación y desorganización hasta ser prácticamente la comunidad autónoma

hacía falta quedar en la cola de la cola para tomar la decisión de acelerar así que pese a que dijeron que no hacían falta grandes recintos de vacunación

a toda una plaza de toros para la vacunación para al día siguiente decir que no que en bizkaia o que en álava no habría grandes recintos y antes de ayer de nuevo

aclárense por favor de paso nos hemos enterado de que en euskadi

que habitantes y de que el viceconsejero de sanidad es un gracioso profesional qué departamento lehendakari

qué afrenta para nuestra sanidad los que no dimiten van de chistosos pero lo que son es frívolos frívolos sin paliativos pero permanecen en su puesto mientras

hasta los empresarios están denunciando los riesgos que para todo representa el retraso de la vacunación pues bien con las ayudas a los sectores más afectados está pasando lo mismo

la última dieciséis millónes a repartir entre miles de comercios de ropa y calzado en total recalcan más de cien millónes en ayudas a diferentes sectores pero la propia cifra

hostelería turismo comercio etcétera respecto a lo que no se toma una decisión eficaz hay desaparición de empresas usted lo sabe

el dinero no llega o es testimonial o llega tarde por tanto está dispuesto como en tantas otras materias a cambiar de rumbo y poner fin al desamparo de tantos sectores económicos en euskadi

y contradicciones su política en la lucha contra la pandemia en todos los sectores afectados eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz prácticamente todos los sectores económicos vascos han sido y están siendo afectados por la pandemia

usted lo sabe bien como sabe que están recibiendo en nuestro caso el respaldo y ayuda de este gobierno y de todas las instituciones públicas la factura que euskadi ha tenido que pagar durante dos mil veinte por la pandemia asciende a seis mil seiscientos cincuenta millónes de unos esto es

todos los sectores se han visto afectados hostelería comercio turismo cultura transporte distribución empresas y personal de comedores

en la gestión de su gobierno hay un trío de componentes y yo se lo quiero decir así para la mayoría de los sectores de este país a los que usted se estaba refiriendo

el desorden la improvisación y el caos y además todo eso

que deja de ser ironía para pasar el choteo porque chotearse de la sociedad

ese viceconsejero a dar explicaciones de que ochocientos centenarios desaparecidos de la vacunación

pero de verdad hay que aguantar y soportar esas impertinencias pero de verdad nos quieren hacer

esos hoteles que están cerrados además casi todos los hoteles cerrados allí mire usted

desamparados por su gobierno es muy real los retrasos en la ejecución de ayudas anunciadas son palmarios y ustedes lo saben y su táctica del cuentagotas ni funciona ni salva empleos ni reanima economía en este país y lo peor nadie cree que ustedes puedan

esta situación por eso permítame que le diga eskerrik asko iturgaiz jauna amaitu da denbora lehendakari jauna zurea da hitza

señor iturgaiz la estrategia en relación a la negociación de los presupuestos yo creo que es manifiesta es clara y cuál

no le he entendido muy bien si se refería a ochocientos centenares o a ochocientos centenarios

todas desamparo no ninguno estamos aprobando medidas desde el primer día

de reapertura de la actividad económica protocolo para la educación presencial reasignación del presupuesto dos mil veinte fondo de prestamos

de los que se han dispuesto setecientos veintitrés ayudas directas desde todas las instituciones a hostelería turismo cultura o comercio planes renove programas de apoyo a las personas familias y colectivos más vulnerables nuevo fondo covid de quinientos cuarenta millónes

ayudas a la vivienda actualización de la renta de garantía de ingresos llevamos

vamos a seguir sufriendo sus consecuencias es cierto que el gobierno ha tenido que cambiar de criterio en muchas ocasiones por la necesaria adaptación permanente

no ninguno cercanía y apoyo sí todo

todas las instituciones están tratando de resolver los problemas con cercanía y dedicación absoluta hemos padecido mucho pero estamos más cerca de la salida y esta es la historia de una lucha sin descanso frente a lo desconocido

y de gran dimensión el resumen es un trabajo continuo de superación de problemas gravísimos cada día todos los días

a cada dificultad a cada día de agua una respuesta una solución esta ha sido y va a seguir siendo la dedicación del gobierno los problemas los conocemos de cerca

en que me lo recuerde en cada pleno de control así podré contestarle públicamente

lo que me disgusta señor iturgaiz es volver a constatar que su criterio y actitud sigue siendo la misma la que quedó reflejada cuando no quisieron sentarse a negociar el presupuesto

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari señorías consejeros nos estamos mal acostumbrando a pasar por encima de los problemas
hablamos de miles y miles de muertos y perdemos el foco en cada una de las tragedias

ajenos al durísimo momento que tantos empresarios y tantas familias están sufriendo y entre las causas destaca la gestión que su gobierno está haciendo de la pandemia no podemos seguir ajenos a los dramas concretos con nombres y apellidos como los de ese hostelero vitoriano que tuvo que elegir entre qué alquiler dejar de pagar y por supuesto ha sido desahuciado han de cerrar sin olvidar que hay empresarios del sector que han llegado incluso a quitarse la vida usted sabe también que es responsable de esta situación de ahí que le preguntemos

que ha decretado cierres confinamientos y otras medidas restrictivas que han condenado a la crisis a miles de personas

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez estamos adoptando decisiones responsables buscando el menor equilibrio entre la protección del bien mayor

y el menor costo posible a la sociedad y se puede hacer una comparativa entre el cierre de determinados sectores y la incidencia en la presión hospitalaria pero en una comparativa por ejemplo en datos del ine se ha incrementado un treinta y cinco por ciento

los procesos concursales en el sector de la hostelería en el estado español en euskadi el dieciséis por ciento señora martínez datos del ine esta incidencia fue total

las medidas establecidas y vuelvo a reiterar el único enemigo es el virus

todas las medidas con rigor y responsabilidad estamos activando todos los medios de ayuda a los sectores más afectados el consejo de gobierno ha vuelto a aprobar nuevas medidas de apoyo económico al comercio se suman a las ya aprobadas para turismo hostelería y comercio el año pasado aprobamos
setenta millónes de euros de ayudas y este primer trimestre hemos aprobado ya treinta y siete millónes más eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

desde que nos estalló en las manos esta pandemia desde aquel primer estado de alarma el panorama para hosteleros empresas turísticas y comercios que dependen del sector

jamás han tenido alternativa los cierres obligatorios les condenaban sin remisión y muchos han perdido todo su negocio y buena parte de su futuro e incluso como le he dicho antes

ayer estuve con una de las víctimas de la gestión de este gobierno uno de tantos hosteleros y nos comentaba todo lo que ha tenido que hacer para adecuar su local a las exigencias sanitarias cómo vive sin saber qué va a suceder a pocos días vista porque el ejecutivo le oculta información esencial

y además sin disponer de los medios para generar con qué pagarlas

de noche se anunció un mes de cierre con tan solo veinticuatro días de antelación de lo que hizo con el género que tenía acumulado

y también comentamos el soplo de esperanza que le llegó de la mano del tribunal superior de justicia del país vasco que le permitió volver a abrir e ingresar otra vez dinero también afeó su gestión señor urkullu evidenciando que en esta pandemia ustedes

sin olvidar ese informe pensilvania recuerde que espero haya podido revisar porque es esclarecedor de demostrarse que los cierres de bares y restaurantes han sido arbitrarios

muchos euros como está costando mucho dinero la opacidad y falta de transparencia con la que se está operando

ese plan de ayudas que han diseñado sin participación externa y que usted sabe que es manifiestamente insuficiente todo esto

que también es una parte importante de nuestro modo de vida el vasco ese que usted tanto defiende nuestra cultura desde inicio de la pandemia no le he oído decir una sola vez que una medida o una decisión ha podido no ser acertada sí hemos escuchado culpar a la ciudadanía tacharnos de irresponsables poner en tela de juicio la gestión que se está haciendo en bares y restaurantes de la pandemia pero nada más

y el sector hostelero y turístico el comercio que ofrece productos a esos servicios les va francamente mal

escasas perspectivas de futuro familias sin ingresos y pobreza y de qué se hace

la argumentación que la acompaña pone de manifiesto su desinterés por todas las explicaciones que he ofrecido que ha ofrecido el gobierno

estos meses y además hoy desliza una falta de respeto nuevamente absoluta a los profesionales que conforman la comisión científico técnica del labi me veo en la obligación de volver a empezar desde el principio euskadi y el mundo entero padece una pandemia global que ha provocado más de dos millónes y medio de muertes es un problema de salud pública

limitar al máximo posible la movilidad y las interacciones sociales especialmente en espacios interiores recuerda usted señora martínez el desconocimiento que llevó a fumigar calles e infraestructuras el debate

como tantas otras cosas esta pandemia implica aplicar severas restricciones tanto a la forma de vida de las personas como al normal desenvolvimiento de negocios

estamos adoptando decisiones responsables buscando el mejor equilibrio entre la protección del bien mayor de la salud y el menor coste posible a la sociedad

reitero erte y su complemento protocolo para preservar la actividad

ayudas directas de todas las instituciones públicas programas sociales de ayuda a las personas familias y sectores más vulnerables la liquidación del presupuesto dos mil veinte

con el nuevo presupuesto hemos aprobado el fondo covid de quinientos cuarenta millónes y cuatrocientos treinta millónes adicionales de ayuda a las empresas convendría que hiciera usted una comparativa entre las ayudas aprobadas en euskadi y las aplicadas en otras comunidades autónomas estamos contribuyendo a contener la situación

le aseguro que vamos a lograr superar esta situación tengo plena confianza en que seremos capaces de reactivar la economía volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo hoy leía en los titulares de un canal de televisión que ha crecido

los procesos concursales en el sector de la hostelería en el estado mire necesitaremos tres años para la recuperación pero comenzará este mismo año eskerrik asko

pues vamos aquí también tenemos la respuesta haciendo malabares

ni de las instituciones porque el problema no está en que las mujeres no sepan que los cuidados siguen recayendo sobre ellas este ocho de marzo o que todavía hoy se mitifiquen las imágenes de la superwoman capaz de gestionarlo todo

y siempre en segundo plano de la suya el problema este ocho de marzo es qué estáis dispuestas a hacer desde las instituciones para que esto no siga pasando

señora etxebarrieta la protección social y la cooperación entre sectores son señas de identidad de este gobierno por eso articulamos una política integral de cuidados

es una inversión social y una herramienta clave para el desarrollo de este país y la organización de la sociedad la reorganización social de los cuidados implica ampliar la responsabilidad pública y también una mayor corresponsabilidad

de las familias de las empresas del tercer sector social de las instituciones de la comunidad en su conjunto eskerrik asko eskerrik asko

hartzeari buruz martínez andrea zurea da hitza buenos días vicelehendakari primero y consejero de seguridad
pregunta es claro y sencillo el veintitrés de febrero en llodio en un contexto de protestas de los trabajadores de tubacex desde el departamento de seguridad se diseñó

tanto es así que el balance no pudo ser peor trece agentes de la brigada móvil y otros tres de protección ciudadana heridos

en este sentido cómo valora usted la actuación cómo interpreta usted los hechos habrá consecuencias de alguna naturaleza para el responsable del dispositivo muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora grisaleña me pregunta usted

el dispositivo organizado la respuesta es sí muchas gracias andrea zurea da hitza
señor erkoreka los hechos son conocidos por todos hubo momentos álgidos en los que a violencia se refiere como por ejemplo entrada y salida de los trabajadores que no secundaban la protesta

sino por la imagen que se ha intentado trasladar del cuerpo policial como si estuviesemos ante un caso de excepción policial

un ataque desmedido por parte de los agentes de seguridad a los manifestantes y nos preocupa esta deriva de intentar criminalizar a los que hacen cumplir la ley a los que mantienen la ley y el orden hubo violencia hubo heridos y detenidos el veintitrés de febrero sí la cuestión es buscar

y la realidad es que a sabiendas de cómo estaban los ánimos entre los trabajadores

móvil número a todas luces insuficiente se podrá usted excusar desde el argumento de la falta de efectivos pero no es así ese mismo día en la base de iurreta permanecieron allí quietos veintisiete agentes más

en conclusión mandamos en unas condiciones precarias a nuestros agentes y luego cuando las cosas salen mal lejos de explicar lo ocurrido de depurar responsabilidades

y criminalizan a nuestros agentes estilo grotesco que en nada beneficia a nuestra sociedad

y se lo pedimos hoy sea contundente en la defensa de nuestros agentes hasta el día de hoy hemos visto tibieza

ningún intento de estudiar el caso y de depurar responsabilidades y eso es importante importantísimo cada día vemos más pintadas carteles insultos incluso disturbios callejeros contra la policía con el único objetivo de acabar con ellos la policía vista como el enemigo público número uno esto a nuestro juicio señor erkoreka es intolerable usted es el vicelehendakari primero miembro notable del partido más fuerte del país vasco

da gasolina a estos movimientos antisistema a todos aquellos que quieren acabar con el principio básico que hace posible la convivencia que son la ley y el orden

o responsabilizar al cargo que diseñó el dispositivo de seguridad está en su mano nosotros

estamos orgullosos de nuestra policía y defendemos sus actuaciones los problemas vienen de la mala gestión de las malas decisiones a la hora de organizar estas actuaciones

con una afirmación rotunda y dos consideraciones previas

no voy a tolerar que afirme que yo no apoyo a la ertzaintza que lo he hecho de manera sistemática siempre que ha sido necesario hacerlo dos consideraciones previas mire ni este consejero

de las restantes personas que forman parte del equipo político del departamento de seguridad diseña operativo policial alguno ninguno lo hacen siempre con mucha más autoridad y rigor las y los profesionales de la ertzaintza que tienen capacitación profesional y preparación para ello segundo

de entablar debates públicos abiertos en relación con el alcance y contenido de los dispositivos y operativos policiales por dos razones en primer lugar porque eso les resta eficacia un operativo

y en segundo lugar porque se puede acabar comprometiendo la propia seguridad de las personas que participan en los mismos

si usted quiere traer a colación y abrir debates públicos en esa cuestión pues no tendré más remedio que acomodarme a su deseo bien contra lo que usted afirma y defiende mire lo que yo sostengo es primero que no faltó ni previsión

ante las situaciones sobrevenidas ambas por cierto absolutamente imprescindibles para responder a conflictos que no se circunscriben a un día sino que se prolongan durante varias jornadas

como está ocurriendo en este caso mire en este caso no faltó previsión porque las jefaturas concernidas en el caso la de la brigada móvil y la de la demarcación correspondiente se estaban reuniendo desde el día nueve de febrero

para diseñar el operativo para trabajar sobre él y para establecer

y este dispositivo operó razonablemente bien sin problemas durante varios días

más que incidentes muy puntuales y todos menores todo sobre la base de un seguimiento conjunto permanente sistemático y una revisión también cotidiana de los dispositivos tampoco faltó capacidad de reacción porque mire el día veintitrés de febrero que es el único que parece que le interesa usted mire cuando se constata a primera hora de la mañana

es multiplicada por seis el número de personas que venían estándolo durante las jornadas anteriores que lógicamente son las que marcan principalmente o inicialmente la previsión

sino que además había entre ellas personas que no formaban parte de la plantilla y que

inmediatamente se activó se reforzó el dispositivo el servicio trayendo recursos muchos otros recursos que tenían sus destinos y sus ocupaciones también todas importantes y además

que está siendo objeto de seguimiento de análisis día a día hasta que el conflicto desaparezca definitivamente

a afirmar tan categóricamente de una manera que creo yo que es excesivamente ligera que esto o aquello

porque tenemos un estado democrático y la ley nos obliga a operar con proporcionalidad con criterio y con proporcionalidad y no hay soluciones facilonas sencillotas

sí en conversaciones de tertulias sí pero en un foro serio parlamentario como este afirmaciones ligeras de ese tipo no se pueden hacer porque supone una desclasificación al colectivo profesional de los equipos de la ertzaintza que están preparando

en lo que llevamos de año meses de enero febrero y varios días del mes de marzo

concentraciones y manifestaciones relacionadas con conflictos laborales

en el noventa y nueve coma nueve por ciento de los casos la intervención de la ertzaintza

observatoria sin apenas intervención efectiva con el objetivo con la finalidad de garantizar la seguridad pública y velar proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades que es a lo que están mandatados constitucional y normativamente

que solo puede ser positiva eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

alestis tubacex eta abar eta abar eta honek ekartzen duen pobrezia eta desberdintasuna y además esto se traduce en incertidumbre

trabajadora y se convierte además esto se traduce en una falta de seguridad de seguridad humana de seguridad para afrontar el día a día hau da euskadin daukagun segurtasun falta handiena la incertidumbre del día a día que afrontan miles de personas que no saben

en ere del autónomo que todavía no le ha llegado su ayuda o de los propios comerciantes por ejemplo en la comarca de ayala

infinidad de actuaciones policiales la mayoría como usted indicaba de forma tranquila pero otras no tanto y sí que le quería preguntar si le parece correcta la actuación de la en la huelga de la estiba en el puerto de bilbao edo zer balorazio egiten duzu bidezkoa ikusten duzun

ertzaintzak egin duen jarduera cuando los trabajadores y las trabajadoras se movilizan se movilizan a favor de sus derechos y de su medio de vida de su puesto

civil pero no es normal como ha pasado recientemente entrar

sin ningún tipo de negociación previa porque no solo reventaron la nariz a un sindicalista antes y después de ese hecho hubo infinidad

que llegue un operativo policial ante un piquete de huelguistas y lo primero que les diga

eso no es normal no sé si está en algún manual policial pero por lo menos normal y no sabemos estas cargas que ya digo que son estos hechos que he relatado no sabemos qué intenciones tienen porque generalmente se producen antes de que los trabajadores vayan a reunirse con la empresa o antes de que los trabajadores vayan a reunirse con el gobierno

de incertidumbre de inseguridad y de nerviosismo aquí estamos varias decenas de personas pensemos en la ansiedad en el nerviosismo en el estrés de estar al límite de perder tu puesto de trabajo ante un despido

no pueden ser operativos policiales intimidatorios tiene que ser el diálogo y la

ezin dugu onartu langileriak gobernu honen partetik tratamendu hau jasotzea no podemos tolerar como ya se ha dicho en esta sociedad que se conviertan conflictos laborales en problemas de orden público por parte de la ertzaintza los trabajadores y las trabajadoras están reivindicando su medio de vida su puesto de trabajo hay que proteger a las personas más en esta situación y no a las poderosas señor erkoreka esta cuestión no es una cuestión en la que hagan falta más pelotas de goma sino más protección

solo interviene en los conflictos laborales solo cuando se producen conductas

penal o administrativo léase entre otros el artículo trescientos quince del código penal

hasta entonces intervienen muchos otros departamentos del gobierno con sus propias políticas atendiendo las situaciones negociando interlocutando y demás la ertzaintza no tiene más intervención que la que le digo cuando se producen esas situaciones especial y entonces

además debe respetar como a usted seguro que no se le oculta un código deontológico muy avanzado muy exigente homologado con los más avanzados de europa

estricta idea de la proporcionalidad en la utilización de los recursos a su alcance no un código además cuya contravención

supone la apertura inmediata una investigación interna como hemos tenido casos recientemente en los que eso se ha podido comprobar investigaciones internas por supuesto que son compatibles con cualquier otra investigación judicial que pueda plantearse como consecuencia

con relativamente frecuencia por parte de la ciudadanía sean de un colectivo obrero en manifestación

que yo creo que se puede afirmar claramente que funciona razonablemente bien

un marco democrático un marco avanzado para la intervención de la

con mecanismos de garantía para corregir desviaciones cuando estas se produzcan

hay mecanismos para corregir esas desviaciones y esas situaciones el marco por tanto es ideal y la respuesta del gobierno no es policial

planteando es multidimensional hay muchos programas sostenidos por muchos departamentos que movilizan muchos recursos económicos atendiendo esas situaciones y la ertzaintza como última ratio solamente interviene

se puedan derivar o se derivan ilícitos contrarios al código penal o a la normativa jurídico administrativa solamente en esos supuestos siempre con proporcionalidad siempre

la de la temporalidad en el empleo público es una historia que viene de lejos pero que tiene devastadoras consecuencias en el presente de la vida laboral de miles

en el ámbito público vasco y que las va a tener aún más en el futuro si no se revierte la situación la tendencia y también el modelo político que nos ha traído hasta aquí una inestabilidad en el empleo público

que afecta negativamente a las condiciones laborales de las y los trabajadores y que es síntoma en nuestra opinión de un modelo basado en la escasa voluntad de crear empleo público

últimos datos disponibles del instituto nacional de estadística la temporalidad en euskadi alcanza prácticamente el cuarenta por ciento en el sector público del total de asalariados muy por delante de la mayoría de comunidades autónomas del estado y muy por encima de la temporalidad en el empleo privado

por encima del sector privado y trece puntos por encima de la media de las comunidades autónomas del conjunto del estado pensamos que si en general no se han hecho bien las cosas

en euskadi pues se han hecho realmente mal en este sentido o realmente bien si tal vez

y que permita la prestación de multitud de servicios y subservicios públicos por parte de empresas privadas para que estas puedan hacer caja

según el propio gobierno vasco en osakidetza el cincuenta y ocho por ciento de interinidad más de veinticuatro mil personas en educación en cuarenta y cinco por ciento

en la administración general un cincuenta y siete por ciento más de tres mil personas en justicia un cuarenta y cuatro por ciento decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en situación de temporalidad cuatro de cada diez trabajadores públicos en euskadi serían en estos momentos trabajadores temporales es decir prácticamente la mitad de quienes trabajan en lo público son temporales en euskadi si a esto le añadimos

para la administración pública vasca a través de conciertos contratas en muchos casos precarias y también con altos índices de parcialidad y de temporalidad pues tenemos

en nuestra opinión los servicios públicos han sido

tal vez de manera consciente porque se buscaba como decía anteriormente un sector público débil y un sector privado que pudiera aprovechar determinados nichos

incluso en algunos casos viviendo en exclusiva de estos los sindicatos vascos vienen denunciando esta situación hace años y han convocado nada menos que una huelga general para el próximo mes de abril en todos los sectores públicos

y también para denunciar el modelo y exigen al gobierno vasco que ponga fin a la política de privatizaciones y externalizaciones también denuncian

últimos años el fraude que se comete con los contratos programa o los contratos de acumulación de tareas reivindican también

las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas estructurales que se negocien reivindican que se negocien y en esta misma línea sitúan también la necesidad de ampliar plantillas

y también regularlas en aquellos ámbitos donde no lo están porque las plantillas en el sector público afirman las centrales sindicales están asumiendo de manera generalizada

insostenible para abordar todas estas cuestiones señora consejera si es que el gobierno tiene voluntad de hacerlo pensamos que es absolutamente necesario

es necesario que el gobierno se siente con los sindicatos de la función pública y negocie y acuerde una hoja de ruta que pueda servir para abordar el problema de la altísima temporalidad

muy grande y que cada vez se antoja más difícil detener las sentencias que usted conoce del tribunal de justicia de la unión europea

abuso de la temporalidad en los servicios públicos no solo en euskadi en el conjunto del estado

y estas personas son en estos momentos las principales víctimas de todas las decisiones y políticas que nos han llevado a estas tasas de temporalidad desbordadas

es cierto del gobierno vasco pero sí el gobierno vasco tiene una alta responsabilidad en esto

que como usted sabe mi coalición forma parte de él deben adoptar medidas para que las políticas para potenciar el empleo público no dejen en la calle a miles de personas en euskadi

es un problemón la semana pasada conocimos la declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria de la ley de policía del país vasco usted lo conoce perfectamente su texto era muy similar a la disposición adicional segunda del proyecto de ley de cuerpos y escalas

a presentarnos hace dos semanas una disposición que estaba destinada o que está destinada a poner en marcha determinados procesos de consolidación en la administración pública vasca más allá de decirnos que no comparten la declaración de inconstitucionalidad que por supuesto ya lo conocemos

lo que pensamos lo que queremos es saber cuáles son las intenciones del gobierno vasco

y para abordar el problema de la temporalidad y el problema del empleo público en euskadi porque esa ley y así se lo dije yo también en la presentación

disposiciones pero podría contribuir a reducirla si se tiene voluntad pero además y así se lo dije yo también es la opinión de elkarrekin podemos izquierda unida se tienen que activar otros mecanismos desde el gobierno vasco para atajar esa interinidad esto era así antes de conocer la declaración de inconstitucionalidad de esa disposición la de la ley de policía vasca y pensamos que con todo sigue siendo por eso para nuestro grupo es importante conocer cuáles son las intenciones del gobierno vasco al respecto queremos saber qué acciones van a realizar ustedes para disminuir

egun on esta consejera es consciente de las altas tasas de interinidad existentes en las administraciones públicas

es una realidad ante la que no he cerrado los ojos ustedes mejor que nadie conocen mis pronunciamientos públicos también en esta misma cámara

no pretendemos eludir nuestra parte de responsabilidad lo que no se puede obviar en ningún caso es que a esta situación se ha llegado como consecuencia en gran medida

nos referimos fundamentalmente a las tasas de reposición de efectivos recogidas en sucesivas leyes de presupuestos generales del estado este gobierno ha defendido que la decisión de los ámbitos en que se admite la tasa de reposición confronta claramente con la capacidad de autoorganización

del estatuto de gernika esto es que la norma estatal

no obstante el tribunal constitucional ha sentenciado

en el ejercicio de su competencia en materia de ordenación general de la economía y en virtud del principio de coordinación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas con la hacienda estatal

ya que tiene relación directa con los objetivos de política económica esto ha afectado especialmente a las administraciones autonómicas

en los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se fue introduciendo una apertura gradual

esta ha sido insuficiente a todas luces por otra parte no se puede obviar

ha obligado a adoptar puntualmente medidas organizativas específicas

como la aprobación de leyes asunción de nuevas competencias

estas medidas han requerido para su puesta en marcha y funcionamiento una asignación extra de recursos humanos a través de contrataciones de carácter temporal

en todo caso en este punto es preciso aclarar que cuando hablamos de temporalidad los datos que se ofrecen tanto por parte de las distintas administraciones públicas como por parte de la representación sindical incluyen

la totalidad de nombramientos de funcionariado interino y las contrataciones laborales temporales para una interpretación adecuada y menos sesgada de los datos

referente a la cobertura transitoria de un puesto de trabajo vacante de plantilla

de ofertarse en una convocatoria pública de empleo y la temporalidad generada por los nombramientos de funcionario interino en sustitución de otro personal funcionario

no voy a extenderme en este aspecto puesto que fue objeto de respuesta en una interpelación previa realizada por el grupo de eh bildu así como tratada en mi comparecencia del veintidós de febrero

insisto en que no es mi ánimo eludir ninguna responsabilidad sino poner sobre la mesa los múltiples factores que derivan en tasas elevadas de interinidad

podamos entender mejor el problema a que nos enfrentamos y podamos plantear las soluciones más adecuadas en todo caso

para presentar las líneas estratégicas del departamento uno de nuestros máximos de nuestros retos principales es el de tratar de reducir lo máximo posible la alta interinidad existente lo dije entonces y lo mantengo ahora

nos centraremos en la cobertura definitiva de aquellos puestos de trabajo vacantes en las relaciones de puestos de trabajo mediante la ejecución de las correspondientes ofertas públicas de empleo tenemos previsto convocar más de diez mil plazas

como ya les trasladé es nuestra voluntad reconocer en la medida de lo posible

mediante procesos que faciliten dicho reconocimiento un colectivo que sin duda aporta una experiencia y un conocimiento de los que sería un lujo un desperdicio prescindir es por ello

hemos planteado en esta cámara un proyecto de ley que incorpora dos disposiciones adicionales encaminadas precisamente a una diferente valoración en el acceso a la función pública

si bien somos conscientes de que la reciente sentencia del tribunal constitucional ha declarado la nulidad de la disposición transitoria décima de la ley de policía vasca disposición

no es menos cierto el firme compromiso de este gobierno en avanzar en la búsqueda de soluciones

de la interinidad en el ámbito de la administración pública tenemos también que poner en valor

los contenidos de la disposición adicional primera de nuestro proyecto de ley en función de ello se posibilita o prevé una mayor ponderación

de la experiencia acumulada en la administración en la que se desarrollará la ope son contenidos que tienen un gran potencial en sí mismos no me voy a cansar de repetir que la apuesta de esta administración de este gobierno para acabar con la interinidad

la convocatoria de ofertas públicas de empleo estas ofertas son las que van a permitir reducir las altas tasas de interinidad que tenemos en este empeño no escatimamos ninguna fórmula y además de poner sobre la mesa esta ley he planteado en primera persona

esta misma semana la urgencia y necesidad de buscar soluciones conjuntas que ayuden a este propósito por un lado reducir la interinidad y por otro reconocer la experiencia del personal interino con una larga trayectoria al servicio de la administración

y ha manifestado públicamente tanto la intención de abordar este problema como una posible reforma del estatuto básico del empleado público

quiero subrayar la idea de que resulta preciso

ofertable a fin de enfocar bien el problema del que estamos hablando y con el objetivo compartido de avanzar en la disminución de las tasas de interinidad y poner en marcha procesos de consolidación con la debida seguridad jurídica

eskerrik asko sailburu andrea hay factores exógenos efectivamente y hay factores que no son

referencia a las tasas de reposición el problema de la temporalidad en euskadi es anterior

por montoro y sus chicos es verdad que efectivamente

a empeorar la situación usted ya conoce

traslada que se ha reunido con el gobierno de españa pero ya conoce que el gobierno de españa ya viene manifestando desde hace meses que está planteando que está planificando que está estudiando entre otras cosas la modificación del estatuto básico empleado público

precisamente para poner coto a la altísima temporalidad e interinidad en el conjunto del estado pero el gobierno vasco también debe cambiar en nuestra opinión su política respecto al empleo público porque como le digo pues las tasas de

no son solo fruto inevitable de la legislación desde luego no son fruto de la casualidad ni de la declaración de inconstitucionalidad

y pensamos que el gobierno vasco en última instancia es el máximo responsable de las altas tasas de temporalidad en nuestra comunidad autónoma porque

tasas de temporalidad con las mismas limitaciones que

en su momento desde el gobierno del partido popular por cierto algunas de ellas contaron con el parabién del partido nacionalista vasco en algunos ejercicios

plantear un debate sobre la responsabilidad del gobierno vasco ya conoce nuestra opinión yo la he reiterado aquí pero nuestra intención era desde luego interpelarle para ver qué medidas van a tomar ustedes en adelante y en especial nos interesa en los próximos meses para comenzar a revertir

situación porque pensamos que aunque haya que modificar factores exógenos como usted dice pensamos que el gobierno vasco desde luego no debería sería un mal asunto si se sentase en el sofá a esperar a que simplemente el gobierno de españa haga las modificaciones que tenga que hacer que revierta algunas de las medidas que nos trajo el partido popular etcétera pensamos ustedes tienen que tener iniciativa usted

algunas de las cosas que son sus intenciones y nosotros le décimos una cosa todas estas cuestiones se tienen que negociar con los sindicatos

creemos que ese es el primer paso que deben de dar ustedes y los sindicatos han empezado a desfilar por aquí para valorar

vino a presentar y una de las cosas que nos siguen reiterando es que falta esa negociación con el gobierno

sobre quién lleva más carga de razón en la falta de negociación o no falta de negociación pero lo que sí es cierto es que siguen reivindicando que se sienten a valorar todas estas cuestiones ahora han convocado una huelga general podemos discutir sobre qué es lo que mueve a los sindicatos a convocar huelgas generales y yo conozco el sindicalismo

por lo tanto yo creo que deben atenderlo y deben sentarse ya no esperar ni siquiera a la tramitación de la ley de cuerpos y escalas no esperar desde luego a las modificaciones que se tengan que hacer en el estado no esperar a nada llamar a los sindicatos sentarse ya en la mesa de función pública y abordar todas estas cuestiones

señor hernández le vuelvo a recordar que una de las cuestiones que han condicionado y derivado en esta situación de alta interinidad que vivimos ha sido la tasa de reposición eso es así por otro lado

ha permanecido invariable y se ha mantenido como una única posibilidad la recogida en la disposición transitoria prevista en el estatuto básico del empleado público pues bien transcurridos ya catorce años desde la adopción de esta medida es urgente proceder a una actualización de la citada normativa

para conseguir la consolidación de un empleo público de calidad una necesidad de modificación que venimos reclamando al gobierno español desde hace tiempo por nuestra parte desde luego tenemos en marcha toda la maquinaria negociadora y como ya le he señalado con anterioridad esta misma semana he atado

para encontrar fórmulas legales que solucionen las altas tasas de interinidad también en la administración vasca según fuentes oficiales del propio ministerio no son mis palabras dicho compromiso quedaba plasmado de la siguiente manera

de colaborar en resolver el problema de la alta temporalidad que viven las administraciones bien reformando el estatuto básico del empleado público o buscando

en todo caso y volviendo a las necesidades propias de nuestra administración

proceder a la reorganización de las plantillas a la redistribución de efectivos y a la gestión planificada de vacantes en este sentido juega un papel protagonista el contenido del proyecto de ley de cuerpos y escalas que más allá de sus disposiciones adicionales

estructura y organiza la administración general en lo que a su personal se refiere

es indispensable para acometer próximas ofertas públicas de empleo que son en definitiva la apuesta de esta administración para reducir la interinidad estas ope permitirán a su vez el rejuvenecimiento de plantillas así como la adecuación de los puestos de trabajo

para un servicio público de calidad por lo tanto señor hernández la respuesta a su pregunta es fácilmente resumible el gobierno vasco va a seguir trabajando para poder desarrollar a la mayor brevedad ofertas públicas de empleo de manera normalizada que permitan reducir la interinidad a la vez que modernizar la administración todo ello por supuesto

el trabajo necesario para poder habilitar procesos que faciliten el acceso de las personas que llevan años dedicando su día a día al servicio público

aportan su conocimiento y buen hacer en todo caso es imprescindible dotar a todos los procesos de la seguridad jurídica necesaria esta necesidad y esta urgencia apelan tanto al legislador vasco

normativa real razonable proporcional y excepcional para poner fin a la realidad de que un muy alto porcentaje del empleo público

sí gracias presidenta consejera consejero

buenos días señora consejera algo falla el gobierno tiene un código ético y de conducta que debe cumplir y bueno parece ser que la actividad usted me comentará de la comisión de ética pública que usted preside ha estado a cero

cuestiones pendientes que analizar no vemos tampoco publicadas memorias de actividades dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veinte o sea habrá alguna razón para esa inactividad

lo que regula el artículo dieciséis del código ético y de conducta

ética pública y vemos que hay una serie de funciones

a observaciones a consultas a sugerencias a puesta en marcha efectiva del código ético a resolver consultas a recibir quejas y denuncias a plantear recomendaciones a realizar un informe anual de supervisión a promover a instancias que procedan a la difusión información crear grupos de trabajo y más cosas que tienen que ver con el funcionamiento

anualmente informe de supervisión guardar secreto de las deliberaciones secreto de las deliberaciones que no es transparencia en relación con el funcionamiento de la comisión

sí que queremos saber consejera cuáles son las razones de esa inactividad de la comisión de ética pública desde hace ya tiempo muchas gracias eskerrik asko

no es cierto que la comisión de ética pública se encuentre inactiva

le puedo asegurar que está desarrollando sus funciones con total normalidad y le estamos prestando toda la atención y rigor que merece una cuestión nuclear para este gobierno

en estos tres minutos y medio que le quedan en lo que hace la comisión de ética pública porque quién controla la comisión de ética pública qué está haciendo vamos a la página vamos a donde tienen además por norma

falla la transparencia el gobierno yo creo que en este sentido con este fallo de transparencia en relación con los trabajos de la comisión de ética pública que usted me dice que está funcionando falla a la propia

pero hemos podido comprobar actividades poco éticas y está claro que ustedes también la administración seguía funcionando

elementos que analizar hay asuntos que analizar y todos lo sabemos asuntos que tienen que ver con cuestiones pendientes las vacunaciones irregulares fundaciones en las que se integra el gobierno vasco que han contratado valor y han perdido millónes de euros analizar las circunstancias las actuaciones

contrataciones irregulares de servicios ya identificadas en el tiempo es decir esas son las cuestiones que tenemos que saber que está analizando la comisión de ética pública no cuántos expedientes siguen abiertos

esos son los elementos que nosotros tenemos que preguntar y tenemos que analizar yo creo que

porque vamos a donde la fuente de la información del gobierno en relación con esa actividad y no hay nada señora consejera yo creo que es bueno

cumpla con el código ético que propició en su momento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna garamendi andrea zurea da hitza

akordioak ixteko este trabajo se concretará en breve en la publicación de varios dictámenes sobre algunas causas que la comisión ha analizado con ese espíritu

en todas las cuestiones que se planteen a la comisión señor barrio la comisión de ética pública de los cargos públicos de la administración de la comunidad autónoma de euskadi tiene un modus operandi muy pautado y tasado

la capacidad de actuación de quienes la integramos y es que una vez se recibe un asunto y se califica como procedente comienza una tramitación

a continuación en función del tema se inicia un trámite de alegaciones de cara a garantizar que la opinión y los datos aportados por la persona interesada también son tomados en consideración por parte de la comisión

si se estima necesario se puede recabar otra información que sirva de base para poder emitir el acuerdo más acorde a los dictados de la normativa de la comisión de ética pública

posteriormente los miembros de la comisión intercambian opiniones

un dictamen que es publicado en la página web oficial de este órgano como bien dice por lo que respecta a la memoria anual de la comisión de ética pública

la normalidad de trabajo de este órgano e impidió su normal funcionamiento

por el que entendemos que no pudo elaborarse la memoria del año dos mil diecinueve en tiempo y forma en todo caso los acuerdos adoptados por este órgano en este periodo

en dos mil veinte no figura ningún acuerdo porque la comisión entendió que para varias de las consultas y denuncias presentadas no había lugar a reproche ético alguno y algunas otras de finales de año todavía están en estudio no obstante como no puede ser de otra manera

y los dictámenes correspondientes es el mejor servicio que podemos hacer a la ciudadanía

que tiene un gobierno y unos servidores públicos en los que puede confiar

estamos trabajando para que dichos informes puedan ver la luz una vez que la comisión está plenamente

gracias presidenta la pregunta es sencilla consejera señora garamendi a la vista de la sentencia del tribunal constitucional piensa usted retirar el proyecto de ley de cuerpos y escalas gracias

me parece que centrar la importancia del proyecto de ley en una sola disposición adicional cuando la virtualidad del mismo es que resulta fundamental para la organización y estructuración de la administración vasca de los próximos años

otsailaren hogeita biko legebiltzarreko agerraldian por lo tanto la respuesta es no

señora garamendi todo lo que ha rodeado a lo que es el proceso de presentación y de trámite de momento

mire cuando hay un problema de esta envergadura tan serio que está reconocido por las instituciones europeas por las instituciones nacionales

y hay que hacerlo seriamente primero análisis de la situación la interinidad es un problema muy serio es un problema

es un problema en el que hay que analizar realmente cuáles son las causas hasta en tres ocasiones le he preguntado que nos diga cuáles son las causas a lo más que ha llegado es a decir que son causas exógenas

pues es verdad que limitaba la posibilidad de convocar más plazas pero por cierto fue una oportunidad en la que podían haber mencionado podían haber repensado cuál es el modelo de la administración vasca es que el problema es que no sabemos cuál es el modelo

hasta en tres ocasiones le he pedido explicaciones hasta en tres ocasiones nos ha remitido a supuestos informes jurídicos que todavía estamos esperando a que nos mande nos enteramos por la prensa

de la supuesta ley esta vasca antipandemia hasta cuándo vamos a estar así hasta cuándo

en segundo lugar hay que hacer un análisis del contexto jurídico y esto es especialmente preocupante llevan una racha malísima

ya les habrían despedido hace tiempo y no les volverían a contratar mire la sentencia del tribunal constitucional

me he preocupado de leerme los informes es que los informes lo pasaban por alto el tema de la compatibilidad con el estatuto del empleado público lo pasaban siempre por alto y lo daban por aceptado en todo caso

es que no hay que hacer informes jurídicos serios y finalmente consejera señora garamendi hay que hacer una propuesta viable una propuesta jurídica viable

y tráiganos a este parlamento una propuesta jurídica viable una propuesta de verdad sobre la que podamos discutir que sea realista y que respete la legalidad y por favor un informe jurídico exhaustivo y no la página y media que nos suelen entregar con todos los proyectos y por cierto en esta materia usted que me llama simplista

que los que firma el señor torre que por lo menos identifica el problema jurídico y analiza la cuestión luego se equivocan también

señor gordillo no voy a entrar al trapo de ninguna

además como responsable del área de función pública de este gobierno quiero romper una lanza en favor de cada una de las personas profesionales que trabajan en la administración vasca independientemente de su situación jurídica administrativa perdón ellas y ellos son el corazón del servicio público que damos a la ciudadanía pero vuelvo al tema que motiva a su pregunta señor gordillo es cierto

de quinta modificación de la ley de policía del país vasco similar

pero no la comparto porque entiendo que hay suficientes motivos para que este tipo de procesos sean posibles este gobierno ha sido proactivo está siendo proactivo

con una interpretación que limita el margen de actuación decisión y organización que debe tener este gobierno el proyecto de ley que remitimos al parlamento va mucho más allá de la particularidad que usted está intentando subrayar

la ley de cuerpos y escalas facilita los procesos de acceso al empleo público adaptando la estructura de la organización administrativa al nuevo marco derivado de la incorporación al espacio europeo de educación superior

una mejor ordenación de los recursos humanos de la administración pública como ya dije en mi exposición ante la comisión parlamentaria esta ley constituirá un paso de gigante para organizar y racionalizar el empleo público y para lograr una administración pública profesional racional y eficaz que responda aún mejor a las necesidades de la ciudadanía por lo tanto reitero esta regulación es urgente y es necesaria en cuanto a la interinidad está fuera de toda duda que es necesario buscar una solución y para eso estamos en política para hablar y buscar soluciones como bien conoce

y función pública el señor iceta y le puedo asegurar que tenemos un compromiso claro para buscar soluciones viables a las tasas de interinidad

larrea andrea zurea da hitza gracias buenos días señoras señores parlamentarios señora consejera hace poco más de un año los vascos
vivimos en zaldibar la que fue quizá la peor catástrofe ambiental de nuestra historia al menos la peor que podemos recordar muchos y una más graves que nos han afectado con consecuencias de todo tipo aun en curso un año después siguen abiertos muchos interrogantes sobre zaldibar que hoy no vamos a cerrar pero hubo una aspiración común después de aquel trágico evitar su repetición hay más vertederos del mismo tipo con similares protocolos de seguimiento e inspección y todos deseamos

hoy venimos a mostrar nuestra preocupación por lo que viene sucediendo en zalla

y por lo que ese modo de actuar en zalla pueda representar respecto a la política de gestión de residuos del gobierno vasco porque su gobierno el gobierno del que forma parte señora consejera ha anunciado el plan de prevención de gestión

nos parece positivo se lo adelanto ya especialmente por ese objetivo de reducir un ochenta y cinco por ciento los residuos que llegan al vertedero o por esas líneas de

en particular la posibilidad de activar un canon de vertido o incineración de residuos que tendría por finalidad evitar que resulte más barato verter

no es algo novedoso la legislación estatal lo prevé desde hace varios lustros la novedad es que por fin nos planteemos aquí su aplicación

esos son los planes los anuncios de su gobierno otra cosa es el día a día la realidad que contrasta con sus anuncios y sobre esto sí creo que debemos aclarar hoy algunas cosas he mencionado el vertedero de las lagunas en este vertedero

se realizó una inspección en los primeros días de junio de dos mil veinte es decir

y cuando toda la sensibilidad debía estar orientada a la prevención de cualquier riesgo similar en nuestro territorio territorio

en zalla se habían producido varios incendios a lo largo de dos mil diecinueve

había encargado un informe a sgs para conocer el impacto de tales sucesos sobre el vertedero en la fecha en la que se realizó el estudio sgs no descartaba combustión en la masa de residuos del vertedero

adicionales trabajos o informes adicionales que deberían determinar entre otras cosas la estabilidad del vertedero la estabilidad de esa masa de residuos

que una empresa especializada hiciera esta recomendación debería

o el propio departamento atendieran en su momento esas recomendaciones

el resultado fue a nuestro entender muy preocupante existían múltiples incumplimientos desviaciones

respecto a las condiciones en las que el vertedero debe desarrollar su actividad que no son otras que las contenidas en la autorización ambiental integrada

y que sirve de referencia a su vez para el control público de tal actividad las desviaciones detectadas no eran temas menores afectaban desde la propia operatividad de los camiones al control de los lodos y su carga de humedad antes del vertido

el control de lixiviados o las mediciones de gas metano parece que no se efectuaban

que hubiera cabras pastando o lo que fuera sobre los residuos con sus posibles implicaciones en la cadena alimentaria no parece lo más grave pero también indica un deficiente en fin conclusión que el gobierno vasco a la vista del informe el grado de cumplimiento de la autorización ambiental integrada a la fecha de la inspección es bajo

que se debía actuar rápido y el gobierno vasco debió de pensar lo mismo porque dio a cespa mediante el correspondiente requerimiento un plazo de treinta días

y los mismos treinta días para además acreditar documentalmente la ejecución de las correcciones hasta aquí lo lógico y lo correcto desde entonces muchas contradicciones parecía urgente que se corrigieran las deficiencias y a nadie hubiera extrañado que se impusiera alguna sanción

desde junio habían transcurrido seis meses

pero confirma que todavía no se han subsanado todas las desviaciones

varias veces mayor que el de zaldibar hablamos de incumplimientos y desviaciones graves del cumplimiento bajo de una autorización ambiental integrada durante meses y más meses un incumplimiento que persistía

de prevención y gestión de residuos y lo que es más grave una situación que no supuso

si se produjo fue imperceptible de hecho los datos indican lo contrario un fuerte incremento del flujo de residuos hacia las lagunas

en términos económicos por eso señora consejera hoy tenemos que interpelarle en este pleno porque con independencia de lo que suponga su nuevo plan que ya debatiremos

y de hacerlo con una celeridad que en este caso no ha existido los riesgos de todo tipo

no pueden permanecer en el tiempo y sobre el territorio durante meses y meses

deben afrontar sus responsabilidades y no parece lógico esperar a que suceda algo grave para exigirlas hablamos de una materia

es fundamental por ello le preguntamos qué va a hacer para corregir y sancionar este tipo de situaciones y comportamientos en los vertederos de euskadi qué va a hacer para actuar con eficacia y en plazos perentorios sin que los riesgos se eternicen queremos saber

con una autorización ambiental integrada plenamente operativa es decir cuándo su funcionamiento será acorde en grado muy alto a la autorización ambiental integrada de modo que salvaguarde a la población de cualquier riesgo ambiental derivado de la gestión del vertedero

persisten a día de hoy ocho meses después de la inspección qué calificación merece

o van a seguir actuando como hasta ahora detectando deficiencias acumuladas durante no se sabe cuántos meses o años que tardan muchos meses

tenemos la impresión de que la actuación del departamento es demasiado laxa y que hace falta incrementar las inspecciones para detectar antes los incumplimientos no solo cuando se amontonan acortar los plazos para rectificar situaciones indeseables que no pueden demorarse del modo que hemos descrito como también se demoraron en zaldibar y tomar medidas extraordinarias de limitación

o de denuncia ante los episodios más graves y todo ello sin esperar a la aprobación del nuevo plan señora consejera porque

años viven con temores que antes no tuvieron de la actuación de su departamento depende que esos miedos puedan ser conjurados racionalmente y para ello necesitamos informes de inspección

y también formas distintas de actuar la administración necesitamos una realidad de cumplimiento alto de la autorización ambiental integrada en en las lagunas en junio de dos mil veinte los informes decían otra cosa

no se ha corregido en zaldibar hace poco más de un año tampoco existía ese cumplimiento alto

y en otros lugares quizá todavía podamos evitar consecuencias graves cambiando el modo de actuar por ello

plantear este debate creemos que es útil porque ese cambio en el modo de actuar solo puede redundar en beneficio de todos será bueno hacerlo cuanto antes y resulta imprescindible
para la credibilidad de cualquier nuevo plan de residuos que el gobierno quiera impulsar muchas gracias eskerrik asko larrea

larrea como usted decía el departamento ha avanzado recientemente en las principales

que marcará la estrategia a seguir por euskadi durante la próxima década no significa que no exista estrategia ahora pero sí queremos plantearnos una nueva para la próxima década

competentes tanto en residuos industriales que toca el gobierno como urbanos en las diputaciones forales y con los principales agentes y actores que se van a ver

esperamos que sea una realidad en el último trimestre de este año los objetivos previstos y quiero empezar por aquí por el gobierno vasco para el año dos mil treinta como usted decía

aumentar la recogida selectiva de residuos urbanos hasta un ochenta y cinco por ciento

y reducir al menos un quince por ciento la eliminación en vertederos se estima que la ejecución de las medidas establecidas en este plan para dar el cumplimiento a los objetivos planteados debe desarrollarse en los próximos diez años

sobre todo a fomentar la circularidad de los materiales es decir sí clasificarlos reciclarlos pero sobre todo reutilizarlos

con que los reciclemos si no los vamos a volver a reutilizar y como usted bien sabe además tenemos aquí en la cámara la ley de administración ambiental que también prevé una actuación en ese sentido todas estas acciones van a reducir de una manera drástica los depósitos en vertedero

más barato no puede resultar más barato a una empresa verter en un vertedero que reciclar los materiales y además vamos a contribuir a mitigar desde luego los problemas que se generan en relación con el cambio climático y buscamos transparencia trazabilidad y sobre todo mejora en la gestión de esos vertederos pero también de todas las instalaciones que vayan a gestionarlos y a reciclarlos por tanto las actuaciones

el reciclaje la circularidad garantizar la autosuficiencia del vertido en euskadi que no tengamos que llevar nada fuera de la comunidad autónoma

estas actuaciones activar el canon de vertido incineración que usted misma comentaba incrementar los recursos de inspección y sanción

un poquito más allá que lo que dice la propia autorización ambiental integrada sino bueno con otro tipo de buenas prácticas que nos ayuden a mejorar la gestión de los vertederos crear esa instalación público privada con una gestión desde luego pública que nos permita garantizar el buen hacer de la gestión de esos residuos y por tanto

es hacer que los trabajos que vayamos a desarrollar desde las administraciones públicas también utilicen esos materiales secundarios y entre todos consigamos terminar con la situación actual si nos centramos en el vertedero de zalla que es de lo que

en ese sentido de acuerdo a asegurar el cumplimiento de todo lo exigido en su autorización ambiental integrada

ha comentado aquí voy a intentar ser lo más objetiva posible y no presumir mala intencionalidad pero quizás sí falta de información

gobierno de cualquiera de los gobiernos y del gobierno vasco en concreto corregir las irregularidades que se detectan en el marco de nuestras competencias y desde luego trabajar

de la inspección y desde luego en que esa inspección de la viceconsejería de medio ambiente

con imparcialidad defendiendo los intereses públicos y en cumplimiento de los planes de inspección aprobados esa es la actuación de la viceconsejería y de los servicios de inspección que además hemos previsto en esa ley de administración ambiental que está en la cámara que se doten con más recursos porque necesitamos ser más ágiles y necesitamos inspeccionar más

respecto a la situación de este expediente concreto señalarle que efectivamente tres y cuatro de junio de dos mil veinte se gira una visita de inspección y se detectan once desviaciones poco relevantes y seis desviaciones moderadas

no se encuentra ningún incumplimiento grave usted hacía referencia que existen incumplimientos graves ninguno en el acta de inspección figuran insisto once

el grado de cumplimiento del vertedero respecto a la autorización obtenida por la empresa fue bajo es cierto de acuerdo

para las calificaciones globales con fecha treinta y uno de julio

se remite requerimiento desde la viceconsejería de medio ambiente exigiendo la subsanación de todas las desviaciones detectadas y con fecha quince de septiembre

y dos moderadas con fecha veintiséis de octubre se remite de nuevo un requerimiento

y con fecha nueve de diciembre se confirma que se ha procedido a la corrección de las cuatro desviaciones moderadas y las dos poco relevantes que quedaban por subsanar por tanto la totalidad

identificadas están corregidas con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte en relación con el propósito de sanción por parte del gobierno vasco indicarle que el incumplimiento de determinadas condiciones de la autorización ambiental integrada puede tipificarse como falta grave para el medio ambiente

grave ni la seguridad del vertedero ni la salud de las personas y esto es muy importante a pesar de que se pueda calificar y que la subsanación o que la calificación en esa inspección de acuerdo con normativa europea pueda calificarse de un grado de cumplimiento bajo

a ese establecimiento de algún tipo de sanción no significa que haya riesgo ni para el propio vertedero en su estabilidad ni para la salud de las personas por tanto bueno tranquilizar en ese sentido a las personas que viven en zalla porque su salud no está siendo puesta en peligro

que se han detectado en este momento pueden trabajarse y pueden

que el expediente ya ha sido trasladado al instructor correspondiente que debe evaluar la pertinencia o no de la apertura de ese procedimiento sancionador una vez que insisto ya se han modificado y se han actualizado y se cumple en su totalidad la autorización ambiental integrada

desde el nueve de diciembre de dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea larrea andrea zurea da hitza

muchas gracias mire hemos querido plantear un debate mirando al futuro y tratando de evitar que se repita de verdad la catástrofe de zaldibar o los meses de incertidumbre que han vivido los vecinos de zalla

que sea lo mismo lo repito no es lo mismo vale quiero que quede claro

y evitable queremos aportar señora consejera de verdad lo que destruye lo que no contribuye a mejorar las cosas es seguir por la misma senda que caminaban ustedes como administración en los últimos años y miren

que dio vueltas y más vueltas en las lagunas desde junio de dos mil veinte y que no sabemos por dónde continuará

por dónde discurre vale no somos nosotros los que afirmamos que la inspección detectó un grado del cumplimiento de la autorización ambiental

eso es lo único que cabe concluir con los datos incorporados al informe y tras el examen de casi docena y media como ha mencionado usted de las desviaciones poco relevantes o moderadas pero había más de docena y media

desde luego eso dijeron ustedes como gobierno vasco por la carta

hace todavía pocas semanas fueron ustedes no mi grupo parlamentario y como fueron ustedes no mi grupo

parlamentaria quienes dieron treinta días a cespa para corregir todo lo desviado aunque luego no se sancione aunque se haya desviado ahora mismo para su posible estudio al operario adecuado en enero

no se había producido ninguna sanción repito pero reconocían ustedes ustedes no nosotros por escrito al ayuntamiento que el plazo dado

carta va carta viene pues el vertedero seguía funcionando el ayuntamiento concediendo licencias para la apertura de nuevas celdas y el ritmo de vertidos acelerándose y esto se puede comprobar y solo un dato los ingresos municipales presupuestados por la actividad del vertedero han crecido

a lo largo de los meses en los que el propio gobierno vasco confirma por su carta que no se han corregido los incumplimientos en todo caso

lo ha sido hasta ahora y lo será también en la moción que plantearemos tratando de impulsar la acción del gobierno en una mejor dirección hasta la fecha muchas gracias

señora muriel quizá estemos haciendo referencia a cosas diferentes y sí me gustaría aclararlo porque le he comentado se detectaron en junio efectivamente esas situaciones que fueron calificadas como en ningún caso graves

todo eso ha sido subsanado pero existe un expediente previo que creo que es al que está usted haciendo referencia que se inicia el veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve

de ese año que se van subsanando que se van introduciendo

los puedo detallar veinticuatro de julio se produce un conato de incendio se comunica se inspecciona el treinta de julio

previamente el cinco de septiembre se había producido otro incendio se visita al día siguiente el vertedero se hacen una serie

se levanta un acta se realizan una serie de prohibiciones de vertido

del incendio bueno existe treinta y uno de octubre otra vez otro conato de incendio y por tanto en ese momento lo que se exige es que se haga una prospección geofísica termográfica monitoreo ambiental orientado a determinar la existencia de posibles zonas de combustión interna así como para certificar las garantías de impermeabilización se le exige a la empresa que realice todo eso y con fecha veinti perdón catorce de octubre del dos mil veinte

el plan de acción que ha presentado la empresa se presenta el plan de acción en octubre se le aprueba ese plan de acción y se inicia la ejecución de nuevas chimeneas de evacuación de gases así como la excavación del área afectada y la reparación de la geomembrana eso es lo que a día de hoy está sin finalizar para lo que se le ha dado un tiempo para que realice para que ejecute

concreto del que usted me hace referencia está siendo objeto de inspección y de seguimiento muy exhaustivo

sin comentar un aspecto al que usted hacía referencia también y es que el vertedero se sigue llenando y el vertedero sigue teniendo licencia de actividad evidentemente el vertedero es un proyecto completo al cual se le dio la autorización ambiental integrada que tiene que hacer seguimiento y que tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo tiene una capacidad y por tanto es normal que se siga llenando el vertedero que siga teniendo autorizaciones puesto que el proyecto ha sido aprobado y tiene su autorización nuestro objetivo más inspecciones hacer un seguimiento mayor generar esa confianza en la trazabilidad del seguimiento de las actuaciones y todo ello insisto ha quedado recogido en dos aspectos uno en la ley de administración ambiental donde se hace un esfuerzo especial para tener

y dos en el nuevo plan de gestión de residuos que pretendemos mejorar nuestras actuaciones y garantizar la seguridad de todas las personas que pueden vivir cerca de

también de esas otras instalaciones que vamos a tener que poner en marcha para generar el reciclado y la reutilización de materiales eskerrik asko eskerrik asko tapia

no debe ser un obstáculo para avanzar en el impulso de las energías renovables

con otros países como bueno o un acuerdo que tenemos con escocia para fomentar el uso de las energías marinas y poderlo traer a euskadi

en la agenda creo que nos podemos permitir el lujo de pararlo mientras nos quedamos pensando bastante retrasados vamos como usted bien ha dicho tenemos objetivos ambiciosos

y eso no significa que vamos a saltarnos ninguna herramienta sino todo lo contrario tenemos instrumentos de ordenación

e instrumentos que nos permiten garantizar que se realizan y se ponen en marcha con todas las garantías medioambientales y usted me lo decía soy consejera encargada de energía también de medioambiente por tanto ambas cosas me preocupan y tengo que cuidarlas pero no porque las tengo que cuidar como mi quehacer sino que sinceramente creo que

toda actividad humana toda genera un impacto ambiental el objetivo es que sea el mínimo posible e incluso establezcamos medidas correctoras que nos permitan continuar realizando esa actividad de la mejor manera posible y eso está garantizado

cuatro parques eólicos en los que hemos realizado mediciones y son factibles para poner nuevos parques cuál es el siguiente paso solicitar la autorización ambiental correspondiente observar si realmente esos parques son factibles de poner en marcha hacía referencia a ordunte por qué porque tuvo una autorización ambiental integrada uy perdón una autorización ambiental negativa es decir no la obtuvo

ese parque eólico los cuatro que queremos poner en marcha van a poder ser una realidad ojalá pero desde luego lo que iniciamos es la tramitación para saber

plantea pero desde luego lo que no podemos es hacer lo que no podemos hacer es pararnos no existe el impacto cero y tenemos que ser capaces de reducir esos impactos y de establecer las mejores tecnologías para que eso sea una realidad no vamos a contraponer y hacer que gane la actividad económica

todo lo contrario usted conoce bien porque suele estar bien informado que en estos momentos existen generadores eólicos ya muy avanzados que en el momento en el que pasan

alrededor suyo las detectan y se paran para no generar ningún impacto por tanto tenemos capacidades para poderlo llevar adelante y con la actuación

queda bien garantizada pero además de los parques eólicos que son relevantes si hacemos referencia a renovables también hemos puesto en marcha dos actuaciones bien diferentes parques fotovoltaicos de una dimensión un poco mayor de la mano

perteneciente al grupo mondragón junto con el ente vasco de la energía

que estamos trabajando y todas las tramitaciones administrativas están llevándose adelante con ello con los dos parques

habríamos cubierto el cincuenta por ciento de nuestros objetivos y son parques fotovoltaicos de una dimensión elevada pero no queremos quedarnos solamente con proyectos grandes y usted sabe perfectamente que también hemos puesto en marcha

democratizar esas energías renovables en la que las diputaciones forales

son parte activa y la ciudadanía todos y todas podemos actuar eta horretan parte hartzeko gai gara beraz

vale hay algunas cosas que no me alguna cosa que no me cuadra señora tapia

que no podemos estar esperando y tenemos que avanzar pero usted me habló el año pasado de que de momento solo estaba midiendo y ahora me está diciendo

ya se han aceptado a trámite pero se ha medido o no se ha medido el viento se ha medido

o sea que algo no me está algo no me está cuadrando ahí eta gero diozu haizea dagoen lekuan dagoen lekuan dago eta ezin garela egon

donde sí creemos no teníamos que haber estado parados si hemos estado parados es precisamente en la ordenación y ahora como hemos andado tarde y ahora como tenemos prisa para implantar las renovables pues ahora vamos a toda leche me parece que nos estamos perdiendo algo de que de repente ha habido esta aceleración no sé si es por una cuestión de que entre esto dentro de los fondos europeos porque es algo extraño porque ya os avisó de que

eólicas o sea las renovables convencionales vamos a decir tenían difícil acceso a los fondos europeos

hay tanta prisa en esto en vez de esperar a en un asunto tan importante como este despliegue

esperar a tener el consenso político y el consenso

y claro digo esto no por cualquier cosa yo no quería entrar a valorar cada emplazamiento en concreto pero es que la cosa tiene su aquel o sea hay varias cosas que hay que destacar o sea tanto azazeta como iturrieta como labraza todos

todos están en araba todos están en araba por qué están todos en araba porque es el sitio donde menos resistencia vamos a tener porque viento hay en los montes de araba y viento hay en los montes de gipuzkoa y bizkaia y no es cuestión

sino aquí sabemos de dónde venimos todos y sabemos que la diputación de bizkaia se plantó en su día y dijo

ni ganekogortas ni orduntes ni nada y entonces vamos adonde menos resistencia vamos a tener porque si vamos y usted me dice que está vigente el instrumento de ordenación del pts eólico primero pues sí pues el instrumento de del pts eólico primero lo que nos está diciendo es emplazamientos seleccionados tenemos una afección global sobre cien sobre cien de cincuenta cuarenta y nueve cuarenta y siete en los parques hechos

el de ordunte tenía uno de cincuenta y siete que es el que tuvo el de impacto ambiental negativo

y en los montes de iturrieta tienen entre un setenta y un setenta y cinco por ciento

claro el viento está donde está y los problemas ambientales están donde están y están detectados y publicados desde el año dos mil dos y ahora resulta que nos vamos a ir

porque allí tenemos mucho viento pues no pues no lo que tenemos que decir es

mira pues igual el cien por ciento del rendimiento que le vamos a sacar no es compatible con la

y tenemos que tener un emplazamiento que tenga algo menos de rentabilidad porque nosotros también estamos invirtiendo un cuarenta por ciento y nosotros también necesitamos tener una rentabilidad

con la licencia social y nos vamos a ir a los sitios no nos podemos ir a los sitios

más problemas entonces por ahí es por donde yo le estoy diciendo que tenemos que llegar a unos acuerdos

que sean una especie de negociación global social empresarial administrativa

y nos intentemos poner de acuerdo pero si vamos con la primera en la frente sin terminar de medir aceleramos y vamos a los sitios que el propio ptse eólico nos está diciendo que son los más problemáticos pues nos vamos a encontrar frontal y además van a tener razón y lo que no puede ser es que en este momento en el que estamos entrando en una sustitución de combustibles fósiles por energías renovables

nos encontremos con que no nos sigue nadie con que no podemos decir a nuestras propias bases ni vosotros ni nosotros ni nadie que esto es importante que esto hay que hacerlo

la gente se va a sentir que lo único que estamos pensando es en pues eso la vieja usanza los negocios de siempre y no puede ser porque no es eso lo que toca y lo que no puede pasar

se convierta en cosas como la respuesta que se me dio es decir el socio mayoritario que es eólicas de euskadi iberdrola no accede a dar la información de los proyectos de haizeindar y esto me lo ha dado

así que vamos a empezar a hacer las cosas bien de una vez eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza

enfadarme y contestarle de malas maneras porque creo que hay ciertas cosas que usted ha dicho que no son tolerables pero voy a procurar

a ese trapo en primer lugar usted hace referencia a que necesitamos energías renovables que estamos muy lejos de los objetivos

en cuanto se plantea un proyecto de energías renovables dos o cuatro todos son pegas todos son dificultades todos son dificultades y entonces ahora

los estudios de impacto ambiental se realizan por algo usted confía plenamente en ellos entiendo los estudios de impacto ambiental se realizan de una forma rigurosa cada vez más rigurosa

adecuada ahora bien también le voy a señalar una cosa porque parece que cuando en un determinado lugar en un territorio algo se califica

aquello es intocable nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad léase usted

lo que dice en la red natura dos mil es que protegemos unos espacios y para ello protegemos unos hábitats de determinados

para conseguir compaginar dos cosas la biodiversidad con la actividad humana y con la actividad económica

luego si confiamos en que todos esos análisis que vamos a hacer de forma estricta en este caso sobre nuestros parques eólicos pero también sobre los fotovoltaicos

positiva podremos llevar adelante ese proyecto puesto que tendremos las medidas compensatorias necesarias para garantizar que lo estamos haciendo adecuadamente

el impacto que existía en el año dos mil dos con la tecnología del año dos mil dos con las garantías ambientales del año dos mil dos son las mismas que las de hoy

pero las garantías son realmente diferentes no nos hagamos trampas en el solitario señor otero

evidentemente los hemos introducido puesto que son energías renovables los hemos introducido pero

egoerari buruz gil jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora consejera con la pregunta de hoy intentamos

que es la situación problemática la situación difícil del sector aeronáutico

y un montón más de ellos indirectos hasta el momento

y no podemos ni debemos dejar de preguntarnos por las causas profundas de esta situación y

de los pedidos de aeronáutica etcétera pero algunos analistas piensan que el sector aeronáutico vasco arrastraba ya de antes deficiencias estructurales que estaban siendo tapadas ocupadas por una demanda que había sido creciente en años anteriores y ya sabemos que cuando la demanda sube

se tapan fácilmente como pasa siempre las crisis rematan lo que ya estaba débil estructuralmente

una de las debilidades más evidentes que arrastraba el sector era la baja inversión en investigación y desarrollo y por eso le pregunto sobre este aspecto vio el gobierno venir esta situación arrastrada

qué hizo al respecto para evitarla qué actuaciones concretas ha llevado a cabo el gobierno para fomentar la innovación y el desarrollo

que hubieran podido si no evitar por lo menos paliar la actual catástrofe eskerrik asko gil jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

no es que es fácil escudarse en la pandemia es que la pandemia ha hecho que la movilidad haya desaparecido en el mundo y que la demanda de vuelos en este momento sea escasa no prácticamente inexistente y si no simplemente si nos acercamos a nuestro mayor aeropuerto a loiu

si no hay compañías volando probablemente esas compañías no compran nuevos aviones no hay pedidos no hay mantenimiento luego no es que se escude nadie en la pandemia es que la pandemia es una realidad y todos los analistas a los que usted hacía referencia no prevén ninguno de ellos una recuperación del sector

de lo que hacían en el año dos mil diecinueve antes del año dos mil veinticuatro veinticinco por tanto creo que no es una excusa es una realidad me habla de que había una situación que algunos analistas decían que la situación

sus resultados los análisis que hace y creo que son no analistas expertos son los que todos los días analizan la realidad y desde luego

por el gobierno vasco que también por el gobierno del estado sino por la propia unión europea a través de iniciativas como la de

que después ha pasado a la nueva convocatoria por tanto

por poner encima de la mesa algunos datos rigurosos en dos mil diecinueve el sector tenía en euskadi cinco mil doscientos cuarenta y cuatro trabajadores pero de estos

que como todos sabemos son críticos para un sector de este tipo es decir de alta tecnología eran un tres coma cinco por ciento menos que en dos mil doce y la inversión en este área

es un sesenta y ocho por ciento privada y un veintidós por ciento pública

del clúster pues efectivamente según el último informe anual de hegan

de dos mil diecinueve previo a la pandemia el porcentaje de la facturación

reduciéndose desde el máximo alcanzado en dos mil once

que antes de la pandemia llevábamos años sufriendo

está muy claro la realidad señora consejera es que pensamos que esta crisis

y sin haber hecho nada relevante para evitarla y ya que hablamos de las inversiones públicas

por ejemplo solo el seis coma ocho por ciento han ido dirigidos a empresas del sector aeronáutico en concreto

espero que aunque tarde se pongan ustedes las pilas dejen de ver los toros desde la barrera medidas eficaces para fortalecer los sectores más críticos de nuestra economía mirando a largo plazo gracias

eskerrik asko presidente andrea señor gil creo que estamos confundiendo términos o no

solo el cuatro por ciento ojalá todas las empresas de este país invirtieran el cuatro por ciento de sus

muchísimo mejores permítame que le diga

a través de sus recursos propios también lo hacen a través de entidades de carácter estatal e internacional pero desde la propia comunidad autónoma existen dos recursos muy relevantes que desde luego ayudan a esas actuaciones y que en algún caso son además le voy a decir no solo ayudadoras sino imprescindibles uno es el cta que tiene dos instalaciones una en bizkaia y otra en álava como usted conoce el centro de tecnologías aeronáuticas que son dos instalaciones que son imprescindibles para

con las diputaciones forales también de acuerdo con el gobierno vasco

esas actuaciones por tanto bueno creo que es una trayectoria desde hace mucho tiempo pero además se puso en marcha en la pasada legislatura el centro de fabricación aeronáutica

que también aúna no solamente las empresas más directamente relacionadas con el sector aeronáutico sino empresas dedicadas a ser proveedoras de ese sector que nos permiten estar desde luego en una posición muchísimo mejor se puede hacer más sí se debe hacer más también

de nuestras empresas pero las de todas del mundo depende de que se pongan en marcha nuevos aviones y hay años

nuevos en marcha evidentemente se baja la inversión pero eso es algo en todo el mundo algo natural y que no significa que las empresas no estén haciendo un esfuerzo

no tengo ninguna duda de que todos hacemos todo lo que podemos y además el estado ha puesto un nuevo plan en marcha en el que también participaremos eskerrik asko eskerrik asko

y yo sabe qué pensé dije huy si es tan bueno para el clima por qué no lo presentan a los fondos europeos dentro de los proyectos next

las risas de la comisión europea se van a escuchar desde tombuctú ustedes a estas alturas con el gas

y oye atención atención que hay un loco en la carretera que va en dirección contraria y ustedes dicen no

porque es así es así como están solos y en dirección contraria seguir adelante con esto meter esto en el contencioso es ir en contra de todo y de todos

incluido el socio de gobierno en contra del clima de las renovables del sentido común se lo dije hace tiempo todo en contra pero ustedes erre que erre con un problema que el pnv creó mantuvo vivo y que quiere perpetuar porque aquí

lo primero dejar de mentir todavía antes de ayer en el fórum económico usted hablaba de bolsas de gas en subijana mentira sabemos hace tiempo que no hay bolsas de gas

y usted lo sabe pero lo hace conscientemente para generar un estado de opinión favorable

lo segundo es dejar de dar soporte a una empresa pública ruinosa

ha vuelto a enterrar más de tres millónes de euros en su balance provisional de dos mil veinte y sigue chupando otros cuatro millónes y pico en los presupuestos de dos mil veintiuno la tercera dejar de intentar

del juzgado el error de hidrocarburos de euskadi que sabiendo que no se podía perforar ahí desde hace diez años la lio por segunda vez la lío

con votos en gasteiz porque en gasteiz en araba

estáis solos y la cuarta usted hablaba en el fórum de recurrir para mantener los derechos vivos

y para qué sabéis que estáis en un game over ahora mismo

ahora lo habéis intentado en madrid con la ley del clima habéis presentado un montón de enmiendas

pero eso ya ha pasado en la ponencia ya se ha votado una enmienda transaccional que ha dejado vuestras enmiendas fuera y que sabéis que todas las pretensiones se van a quedar ahí

aunque explorarais sabéis que no vais a poder explotar así que ya está o sea esto se ha acabado hau da bukatu da bapo

ibilbide gehiagorik es un jaque mate es un jaque mate y ni siquiera os estáis dando cuenta y esto ya empieza a ser todo un despropósito eso sí por el camino malgastando tiempo y haciendo mal gastar tiempo y dinero de todos

ni aunque lo ganéis y lo sabéis toca bajarse de la burra y a otra cosa mariposa

la referida al gas le decía que desde el punto de vista de los derechos qué derecho

una sociedad de la que somos gestores como institución pública para garantizar precisamente la gestión pública de ese derecho de exploración eso por una parte convendrá conmigo por mucho que no le guste que efectivamente cuando hablamos de que es un gas de kilómetro cero tenemos primero que explorar para saber si existe ese recurso si existe suficiente y si lo podemos extraer porque puede darse el caso de que los estudios geológicos nos digan que sí pero cuando hagamos la exploración no sea posible y

decidiremos si lo sacamos o no pero es nuestra obligación como administración pública saber si existe o no dos la unión europea a la que tanta referencia hace usted

lo que dice es que el gas natural hasta el año dos mil cincuenta donde vamos a ser neutros en carbono o ese es nuestro objetivo el gas natural tiene que ser la energía de transición dicho esto y ustedes lo aceptan y los compañeros de podemos también de elkarrekin podemos lo aceptan estamos en lo mismo el gas que lo traigamos de otro sitio entonces usted me dirá supongamos que se saca con la misma tecnología y que las emisiones de gas son iguales aquí

el gas piensa usted que hay que traerlo hasta aquí las emisiones de ce o dos son mayores o menores qué es descarbonizar y qué es luchar contra el cambio climático producir emisiones de ce o dos

por tanto si pensamos que realmente ese es nuestro objetivo vamos a perseguirlo de verdad con eficiencia energética con renovables con gas natural

que desde luego europa la está empezando a impulsar y donde también queremos estar cuatro pilares en los que vamos a estar en los cuatro en los cuatro porque los cuatro son importantes y nos van a ayudar desde luego a descarbonizar y a ser neutros en carbono en el año dos mil cincuenta ahora lo que no me vale es decir aquí no

porque aquí se emite ce o dos y aquí es un recurso que desde luego no es sostenible ahora bien si viene de trinidad y tobago que vaya usted a saber cómo sacan ese gas

ese es mucho mejor pero ese es importante para euskadi sin ese gas

vamos a dejar de ser permítame la expresión hipócritas y vamos a trabajar en todas y cada una de las necesidades para de verdad descarbonizar nuestra economía ese es nuestro objetivo

fin en lo que ahora mismo estaba dándose como debate nos parece absolutamente vergonzante e hipócrita que se hable una semana antes de

mencionaba ahora y a su vez decir esta semana que se va a interponer el recurso para seguir con las exploraciones de gas

un consenso general tanto por parte del ayuntamiento de gasteiz y del gobierno municipal así como de su socio de gobierno y del conjunto de la sociedad alavesa en cualquier caso yendo a la pregunta concreta que le queremos

el gobierno vasco para que las empresas contaminantes no supongan un peligro para la salud y para que la ciudadanía ejerza su derecho a la participación y acceso a la información

momentu honetan proceder a hacer la inspección absoluta de las autorizaciones ambientales integradas que se dan de forma específica y de forma especial y detallada para cada una de esas empresas como usted bien sabe donde se recogen las mejores prácticas de acuerdo con las comisiones técnicas

a las exploraciones de gas de subijana decirle que su partido en los procesos de negociación han asumido

esa asunción de ese acuerdo denota que ustedes no pretenden por lo menos a medio plazo incidir en esas cuatro patas sino en tres si no un asumiría su partido político realizar más exploraciones de gas ni permitir licencias respecto

lo que se refiere a la pregunta que le hemos formulado son innumerables los movimientos ciudadanos el movimiento contra el fracking que ya le mencionaba zaldibar

gurasos ciudadanos de erandio y ciudadanas de erandio y durango en relación con la calidad del aire

en relación con glefaran y las irregularidades y la contaminación que desarrollan bai respecto a la vertedero de zalla en fin estas plataformas ciudadanas que se constituyen para dar respuesta al incontrolado ejercicio por parte determinadas empresas contaminantes en este país de su no surge por efecto atmosférico estas plataformas surgen para dar respuesta a una inquietud ciudadana respecto a lo que el gobierno vasco no desarrolla que son los protocolos de control necesarios y exhaustivos en este sentido vamos a tramitar o estamos ya

de cara a la ley de administración ambiental que es la ley que debe controlar a estas empresas

para que respecto a las enmiendas que nuestra formación política pueda plantear estas puedan tener mayor o puedan ejercer mayor control respecto

del derecho a la información que estas plataformas piden insistentemente respecto a estas empresas contaminantes decirle que en fin la existencia de tantas plataformas tantas denuncias públicas y ahora también en relación con la cuestión de las exploraciones de gas denotan que en fin tácitamente o en su defecto ya sea por omisión el partido nacionalista vasco o su departamento en concreto en fin
es un serio riesgo en relación con la contaminación en este país eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

en cualquier caso en relación a las exploraciones de gas no más

por cierto vigentes con autorización del ministerio de transición ecológica y reto demográfico podemos utilizarla no más significa que las que tenemos sí

las mejores prácticas de acuerdo con las comisiones técnicas de la unión europea están introducidas en las autorizaciones ambientales integrales correspondientes a cada una de las empresas

que automáticamente nos van remitiendo los datos por lo tanto se hace una revisión general y se hace una revisión exhaustiva de cómo se están cumpliendo existen además como usted bien conoce

que existen en movimiento con una serie de determinantes muy muy exhaustivos y se han analizado y se han observado mejoras y se ha trabajado con las empresas y la última en el goierri con unas emisiones que existían de níquel en tres años hemos conseguido reducirlas en el noventa por ciento luego hay voluntad por parte de departamento sí

pero existe una normativa que se está cumpliendo a rajatabla en cuanto a la participación también hay una ley de transparencia que nos obliga a dar esa información y no nos consta

a ningún colectivo ciudadano que así lo ha solicitado por tanto vamos a continuar trabajando por dar la mejor información y ser absolutamente transparentes en cumplimiento

de las mejores que existen en este momento no obstante hay posibilidad de introducir otra serie de aspectos que nos van a permitir atender a muchísimas

hay algunos de los aspectos que se han mejorado en durango por ejemplo que se han detectado como consecuencia de las mediciones de la calidad del aire que han sido incorporadas como consecuencia

en la unión europea en esas comisiones técnicas como consecuencia de algo que se está realizando en euskadi por tanto no es que queramos

muchas cosas que mejorar evidentemente pero desde luego creo que en este sentido se están dando muchísimos pasos y se está mejorando desde muchos aspectos todas esas emisiones

integradas en esa autorización y que se inspecciona de forma constante

y vamos a continuar trabajando con todos y cada uno de los colectivos que así nos lo hagan llegar ofreciéndoles toda la información eskerrik asko eskerrik asko

ante la importancia del proyecto víairun para el territorio de gipuzkoa y concretamente para la comarca del bidasoa

saber qué posición tiene el gobierno vasco y concretamente su departamento respecto al mismo y qué líneas de colaboración y apoyo han puesto en marcha o pretenden

señor soto entiendo que habiendo sido concejal hasta hace prácticamente cuatro días sabrá usted perfectamente todos los movimientos y todas las relaciones que existen

entre todo lo que es la corporación municipal y los diversos departamentos del gobierno vasco que están implicados que no solamente es el nuestro y desde luego sí me gustaría hacer una un breve repaso que este proyecto tuvo sus orígenes allá por dos mil once

gobierno municipal diputación foral de gipuzkoa gobierno vasco y el gobierno del estado el ministerio de fomento se firmó el once de marzo y desde luego

adquirimos una serie de compromisos y nos ha correspondido trabajar desde cada una de las iniciativas y desde luego le puedo decir que desde el gobierno vasco todas y cada una de las iniciativas que se consideraron se han puesto en marcha y se han trabajado hemos ido haciendo todo lo que nos correspondía todo

el gobierno vasco trabajó ha trabajado y trabaja con la voluntad de cumplir y de enriquecer de hacerlo mejor lo hemos trabajado y la última de las actuaciones y usted la conoce fue la de integrar el topo la estación del topo dentro de todo lo que es el proyecto víairun

introducirlo hemos hemos adquirido esos compromisos y los hemos que cumplido bueno creo que

no ha llegado el tren de alta velocidad en el momento que se requería y además se ha producido un recorte por parte del ministerio de fomento de adif respecto de los compromisos iniciales

por tanto bueno ya que forman parte del gobierno en el gobierno municipal y además en el gobierno del estado a quien le compete esto pues quizá sería interesante que cada una de las administraciones cumpliera todos los

que nos parece sorprendente que un proyecto de tal envergadura que efectivamente ahora mismo va a desafectar sesenta y cinco mil metros cuadrados de playa de vías para su desarrollo urbanístico pero que en su conjunto suponen trescientos mil metros cuadrados de desarrollo urbanístico que va

y a su vez teniendo en cuenta la necesidad de la comarca respecto a el empleo y también el desarrollo innovador sorprendente y esto ha sido algo que se ha verbalizado por todas las fuerzas políticas del consistorio

sorprendente que no haya sido incluido o como mínimo no se haya dialogado con el ayuntamiento de irún respecto a la inclusión de este proyecto en los fondos europeos

ha pasado con otros proyectos por vía directa ya digo teniendo en cuenta la importante relevancia que tiene este proyecto en términos de generación de empleo de innovación y también de recuperación del espacio ferroviario de irún

en relación con lo que tiene que ver con los trámites de la homogeneización del espacio ferroviario con la inclusión de las líneas de topo efectivamente ahí sí que se están dando pasos pero recordemos que inicialmente inicialmente no se planteaba la homogeneización de las líneas del topo con las líneas ferroviarias y con la estación

va a construir en el espacio ferroviario de vía irún sino que se planteaba el soterramiento una opción absurda absurda y la única razón por la que se planteaba esa posibilidad era por la obcecación de la

en esa persecución permanente que hace de aquellos espacios no gobernados por su partido porque irún es una ciudad que ya no solo por lo que tiene que ver con la inclusión de este proyecto en los fondos europeos ha venido padeciendo en innumerables ocasiones también respecto por ejemplo a la variante sur que ahora se está desarrollando

hace ya unos cuantos años respecto a la no necesidad de hacer esta variante sur en una ciudad de tanto tránsito en fin simplemente decirle que consideramos

en su globalidad no existe la voluntad de impulsar este proyecto como debiese hacerse cosa que sí se hace con otros proyectos de la capital y también decirle que esto

de gipuzkoa que tiene que ver con el desequilibrio territorial permanente al que nos llevan en ese territorio histórico y en el conjunto de euskadi

y en los fondos europeos se ha visto incentivando proyectos muy concretos siempre ligados a las capitales y dejando de lado a ciudades medias y pequeñas en la participación

de estos proyectos que vienen a impulsar y a generar empleo eskerrik asko eskerrik asko soto jauna tapia andrea zurea da hitza

era necesario que la estación del topo estuviera perfectamente integrada dentro de la estación internacional allí está allí está y hemos trabajado para que así sea si trabajamos además desde el punto de vista de la gestión de esos suelos como usted bien conoce por haber sido concejal existe una sociedad denominada zaisa que se modificaron sus a propuesta del ayuntamiento de irún todos los que estamos allí presentes que somos las tres instituciones así lo aceptamos las tres instituciones participamos en esa

y formamos parte intrínseca de la gestión de ese proyecto no es que nos sumemos después es que estamos desde el principio

existen posibilidades de desarrollo como usted bien dice de tratar de hacer desaparecer esa brecha que existe en irún y de un desarrollo importante desde el punto de vista de un parque industrial empresarial vamos a decir un parque empresarial con diversos y lo hemos tratado como usted bien sabe con el alcalde y se está tratando también desde la parte de la diputación foral de gipuzkoa poniendo a disposición todos los instrumentos que tenemos por tanto lo he dicho antes con el señor otero con los proyectos next

un proyecto es importante o deja de ser importante porque esté o no esté en un listado un proyecto es importante si de verdad creemos en él y le vamos a destinar recursos y tenemos

existen recursos desde luego en esa sociedad de la que forma parte del gobierno vasco y existen otros instrumentos

la voluntad de hacerlo no es que es voluntad es que existe compromiso eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

debe completar el marco jurídico general de la implantación y en su caso ampliación de los grandes establecimientos comerciales y lo va a hacer

a la filosofía de la ley aprobada por unanimidad en este mismo parlamento en junio de dos mil diecinueve

ambientales y de ordenación del territorio al objeto de que tanto la ley como su decreto de desarrollo tengan la mayor seguridad jurídica eskerrik asko

inicial se ha anunciado la consulta pública con carácter previo

este paso es preliminar y aspira a recabar la opinión de personas y organizaciones representativas potencialmente afectadas por este desarrollo normativo

pero le aseguro que se trata de un trámite que se realiza de forma habitual

el proceso continuará después con distintas fases entre las que se encuentra la de información pública

de toda la ciudadanía no confunda usted la consulta pública previa con la fase de información pública porque son cosas distintas

este debe profundizar en la ley una norma que precisamente

cuyas limitaciones administración ampliación de esas superficies fuera de los núcleos urbanos fueron anuladas por parte del tribunal superior

en dos mil quince por entender que se trataba de una limitación de índole económico como usted bien sabe este no es un tema pacífico y afecta en materia jurídica

local autonómica estatal o incluso europea y por eso el decreto ahora en redacción tiene la voluntad de demostrar que los criterios para aceptar o no la implantación

fuera de los núcleos urbanos responde estrictamente a razones de ordenación del territorio para un desarrollo urbano social

sostenible y no a otros de carácter económico mercantil prohibidos como usted bien sabe por la normativa europea no le quema la menor duda de que este departamento

de respetar la ley aprobada por esta cámara y de hacerlo despegando las dudas jurídicas que han podido surgir en otras administraciones y lo haremos además elevando la consulta pertinente a la comisión europea para ratificar que el decreto cumple con la directiva comunitaria y la jurisprudencia del tribunal superior de justicia europeo y

hablar aquí en este debate de esta ley o de este decreto

es dar cuartos al pregonero y no hace ningún favor

del decreto que aprobemos o de la propia ley porque nosotros no apoyamos con este decreto ni con la ley ni el pequeño comercio

planteando es un desarrollo sostenible y equilibrado basado en razonamientos ambientales y de ordenación del territorio eso es lo que hacemos eskerrik asko

eguerdi on denoi aquí ha habido una masacre hemos contribuido a la paliza más grande de la historia

hace cuarenta y cinco años aquí en gasteiz después de disparar más de mil tiros de gasear y apalear

que abarrotaba la iglesia del barrio de zaramaga vinieron para sembrar la desolación para generar sufrimiento desolación y sufrimiento el de la violencia policial el del terrorismo de estado

que sirva de gran lección para todo el país en los meses próximos esan zuen azkenak berrogeita bost urte espainiar gobernuak

hace poco más de un año víctimas de aquella masacre la asociación

sindicatos historiadores académicos profesionales personas de a pie

gara esta iniciativa redactó un proyecto memorialístico para que la iglesia

ahora en desuso se recuperara como símbolo de aquella masacre memoria gara ha elaborado una propuesta

relacionado con la memoria de las víctimas de la masacre con los valores por los cuales luchaban de justicia social de empleo digno

y cómo no por la verdad por la justicia por la reparación de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron contra ellos en este libro

recién editado creo que recién venido de la imprenta creo que tiene usted

se recogen las líneas generales de ese proyecto que ha venido dibujando esta iniciativa una propuesta con la que pretenden sentar las bases sobre los contenidos

repito que entiendo que las instituciones tienen que tener un papel determinante en este proyecto pero quiero saber cuál es el papel que le otorga usted a las víctimas y organismos sociales

vitoria el movimiento memoria gara saludó ese documento como un primer paso sin embargo consideramos que no ofrece demasiada concreción sobre los compromisos adoptados y por eso le hemos registrado algunas preguntas escritas al respeto

ese acuerdo de utilización de la iglesia de zaramaga y queda por definir y consensuar el proyecto memorialístico establecer un calendario de trabajo y claro está dotarle de recursos económicos y creemos que ahí debe de estar

la iglesia de zaramaga no es un simple contenedor frío de objetos es un símbolo con alma que debe permanecer vivo renovando los sueños anhelos de democracia y justicia social de los hombres y mujeres

aquel tres de marzo de mil novecientos setenta y seis memoria gara

dinámico activo para mantener esas iniciativas que han venido además desarrollando en los últimos años iniciativas didácticas educativas

para que los más veteranos no olviden lo que sucedió y para que los más jóvenes puedan conocer me atrevo a decir que memoria gara

de la memoria quiere un hogar para la memoria en la iglesia de zaramaga donde la memoria habite donde crezca

y sea además transformadora la iniciativa memoria gara dice textualmente no contemplamos otro escenario que no sea aportar en este proceso implicarnos tanto en su diseño como en su gestión

nos une a todos y a todas un objetivo compartido que vitoria gasteiz y las víctimas de aquel trágico y luctuoso tres de marzo de mil novecientos setenta y seis tengan el espacio memorial que merecen

en el imaginario de todos los demócratas vascos pedro mari martínez ocio

chaparro josé castillo garcía y bienvenido pereda moral y las cientos de personas heridas aquel día merecen mucho más con la jornada al año en nuestro recuerdo merecen ser memoria viva por muchas razones

a la memoria al reconocimiento a la reparación y a la justicia merece ser memoria viva porque entre todos y todas queremos construir un futuro con memoria

han pasado cuarenta y cinco años desde que el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis un tiempo

pero sí es verdad es mucho tiempo demasiado tiempo denbora gehiegi egia

demasiado tiempo sin la necesaria autocrítica y la asunción de responsabilidades por parte del estado por la utilización

en vitoria gasteiz y demasiado tiempo sin una justa reparación

todos y todas éramos conscientes había un escollo de difícil solución lo sabían ustedes y también las instituciones éramos conscientes de que el memorial del tres en marzo solo pedía tener una ubicación

era el único escenario que podía dotar de su verdadera significación al memorial del tres de marzo y ese espacio estaba consagrado a otros fines fines incompatibles con el del espacio memorial hasta dos mil catorce la iglesia tuvo dedicada su función original

a la fundación san francisco de asís con una actividad religioso cultural centrada en el belenismo

era plenamente y es plenamente consciente de que el objetivo no era nada fácil

de los usos a los que estaba destinada y hacer posible una cesión de uso para la ubicación allí del espacio de la memoria y a eso nos hemos dedicado durante los últimos años meses

milaka gasteiztarren sarraskiarekin reconozco con rotundidad que la iniciativa social ha trabajado mucho en diversas iniciativas vinculadas al proyecto pero le puedo asegurar que las instituciones también y al final el trabajo ha dado sus frutos y se han creado las condiciones de oportunidad para que el primer gran objetivo

posible a este primer objetivo y para que se pudiera cumplir el acuerdo que el gobierno vasco el ayuntamiento de gasteiz y la diputación foral de araba junto con el obispado de vitoria gasteiz suscribimos que el pasado día dieciocho y que fue definitivamente fraguado en fechas recientes

el presente protocolo de intenciones tiene como objeto general la colaboración interinstitucional para el desarrollo del centro memorial de las víctimas del tres de marzo con este objetivo las partes acuerdan la creación de una fundación

y gestione el centro memorial de las víctimas del tres de marzo en la iglesia de san francisco de asís

con este objetivo la diócesis de vitoria cederá el uso de la iglesia de san francisco de asís a la fundación que se cree con ese fin en los términos que se dispongan

política como algunos respondiendo a no sé qué intereses y sin ningún conocimiento de causa han tildado fue

un final que despeja la incógnita más importante que bloqueaba el proyecto

el de la iglesia de san francisco un acuerdo que nos abre a un nuevo futuro y a nuevos objetivos de hacer realidad el proyecto

como no podía ser de otra manera con la iniciativa social usted lo ha dicho quedan muchas cosas por concretar por definir y por presupuestar y ahora leeré textualmente y junto a este lo que aparece en ese convenio y lo que además yo he dicho

y un reconocimiento también al trabajo que viene desarrollando la iniciativa social en relación con el tres de marzo

auzolana desde el liderazgo institucional y el reconocimiento y la participación de la iniciativa social con estas dos premisas

del tres de marzo tiene que estar asegurada estas fueron mis palabras el día dieciocho de febrero y son mis palabras y mi compromiso hoy aquí en esta sede parlamentaria

el esfuerzo y el compromiso que usted nos ha trasladado aquí

agente social porque sí que puede haber una tentación de desarrollar un proyecto de estos

a las víctimas al asociacionismo o a los sindicatos no digo que lo haya digo que puede haberlo no y tal vez además ha sido algo pues que se ha querido airear desde algunos medios de comunicación no sé con qué interés en cualquier caso sí que será más difícil

caso creo que es la forma más satisfactoria sin duda de hacerlo me habla de una fundación o de alguna forma análoga intuyo que igual al decir esto piensa en el modelo del

me parece que es más cosmético que real la participación ahí del asociacionismo pero en cualquier caso hay modelos y hay otros

se pueden llevar a la práctica de una forma exitosa

démosles vida démosles memoria pedro maría francisco romualdo josé

no se va a desarrollar de espaldas a la iniciativa social no sé cuál va a ser la forma jurídica que vayamos a utilizar usted ha dicho hay varias veremos cuál es la que

tenemos depositada la voluntad popular y también la colaboración con la iniciativa social y de eso no le quepa ninguna duda nuestra relación con las asociaciones de

y con los sindicatos a los que pertenecen las víctimas es fluida estamos trabajando de una forma

el pasado veintinueve de enero tuvo lugar una reunión entre representantes del ayuntamiento de vitoria gasteiz de la diputación foral de álava y del propio gobierno

por parte de nuestro departamento acudió a la reunión los representantes más cualificados a nivel

y la propia directora de gogora y en esta reunión de trabajo memoria gara nos presentó ese proyecto que usted nos ha mostrado

y las conversaciones van a continuar en un nuevo contexto de trabajo entre todas las partes

como le decía hemos estado trabajando y vamos a seguir haciendo mucha cocina no tenga

y le digo más valoramos muy positivamente la reacción que ha tenido memoria gara ante el anuncio de colaboración institucional y en este momento las líneas de trabajo son varias la liberación de los espacios y en este momento hay allí unos belenes la constitución de esa entidad jurídica veremos lo que va a ser

de ese espacio con el obispado el diagnóstico sobre la situación del edificio arquitectónicamente tiene alguna serie de deficiencias que habrá que valorar y entre ellas lógicamente decidir qué proyecto vamos a llevar adelante usted hablaba de hogar veremos lo que vamos a poner ahí

estoy convencida de que por encima de las diferencias tenemos muchísimas cosas que nos unen en esta cuestión

y eso también nos une en base también a principios que deben sustentar el proyecto

una memoria para la verdad una memoria democrática e inclusiva una memoria concebida como espacio vivo

y también como un espacio para la investigación para la reflexión el debate la formación y la sensibilización una memoria documental experiencial

que vincule el pasado el presente y el futuro y estoy segura de que nos une también un propósito común y bueno yo estoy segura que además usted y yo queremos blindar este proyecto de posibles instrumentaciones y manipulaciones la memoria del tres de marzo debe ser una memoria de todos y todas para todos y para todas

muchas gracias presidenta consejero consejera señorías

muy breve aunque sea una interpelación porque lo que quiero es el análisis

planteamos recién con el deporte escolar con la competición el análisis que hace su departamento el departamento

ya que la dirección de deportes pues bueno tendrá

vaya pasando juntamente con otras instituciones no me cabe ninguna duda y también con la situación que estamos viviendo ya que se están dando pasos en el sentido de la competición deportiva yo me refiero en este caso al deporte escolar ya se han dado pasos en relación con y además desde un inicio en relación con el deporte profesional semiprofesional en relación con la competición

federado en relación con la competición lógicamente con los entrenamientos y sus limitaciones y estamos en la fase del deporte escolar sin competición con

y a nosotros pues bueno como les pasará también a usted y al departamento y a otros grupos

volverá la competición también y el estímulo de la competición sobre la práctica deportiva al deporte escolar eso forma parte también de ya sabemos todos cómo se gestiona y cómo se regula el deporte escolar pero en cualquier caso

centrales donde van a planificar las medidas que se van a ir dando en relación con este tema aún están limitados los entrenamientos no hay competición en el deporte escolar

reanudación en esa tendencia a la baja en la que estamos de la reanudación

se dice literalmente reanudación de la competición cuando haya tendencia a la baja y entonces en ese sentido ya hemos visto que se abrió

las posibilidades de mejorar el grupo a ver si puede ser así igual hasta pronto tenemos alguna noticia en ese sentido pero sí que me gustaría un planteamiento o un análisis de

la competición como estímulo del deporte escolar ya sabemos que queda poco tiempo que queda poco tiempo de curso que queda poco tiempo de temporada pero en cualquier caso dentro del deporte

interesarnos y de responder a las preguntas que nos hacen colectivos implicados en el deporte escolar pues a ver qué consideración hace su departamento en relación con este tema muchas gracias

a la reanudación de la competición deportiva escolar en euskadi y le respondo como no podía ser de otra forma el gobierno vasco cumplirá y hará cumplir

como sabe desde la declaración de la emergencia sanitaria en euskadi el lehendakari y la consejera de salud han ido publicando diferentes órdenes y decretos

a la transmisión de la covid y quiero recordarle que todas las decisiones adoptadas por el lehendakari todas han estado basadas en las recomendaciones y propuestas planteadas por el comité técnico del labi así ha sido y así seguirá siendo y permítame recordarle que este técnico este comité técnico

y evaluación sanitaria de salud el coordinador de los servicios sanitarios los vicedirectores de salud pública y adicciones el jefe del servicio de microbiología del hospital universitario donostia

el director de innovación sanitaria de bioef la directora de salud pública y adicciones el coordinador de los programas de seguridad del paciente

el viceconsjero de régimen jurídico del departamento de gobernanza pública y el viceconsejero de sanidad todos y todas ellas coordinadas por el secretario general

estos son los y las profesionales del sistema vasco de salud que han acordado las recomendaciones y propuestas sobre las que el labi y en última instancia el lehendakari han ido adoptando sus decisiones también en el ámbito del deporte escolar

todo tenor que en cada momento se han podido desarrollar desde mayo del año pasado en lo que respecta al deporte escolar conviene recordar en este punto que según la ley

autónoma son las diputaciones forales las instituciones competentes para el desarrollo normativo y la ejecución de la normativa en materia de deporte escolar en coordinación

la misma ley asigna a las instituciones comunes la regulación de las bases y principios generales del deporte escolar de su régimen disciplinario deportivo y de sus competiciones

primero en las propuestas realizadas por los responsables técnicos sanitarios y segundo

máximos representantes de las instituciones competentes en materia de deporte escolar este es el marco en el que el lehendakari y el gobierno han ido tomando decisiones la primera gran decisión vino impuesta a mediados de marzo de dos mil veinte cuando a través de un real decreto

en todo el estado y decretó el confinamiento general y domiciliario una situación

el cierre total de todo tipo de actividades hasta el mes de junio

general en el que no solo el deporte escolar también la actividad física

estuvo suspendida y prohibida a partir de ese momento comenzó un proceso desescalada

finalizado el primer estado de alarma y dentro del respeto a las competencias que corresponden a la comunidad autónoma en julio de dos mil veinte gobierno vasco y diputaciones forales decidimos crear

estamos en julio de dos mil veinte seis de julio

seis repito seis de julio tasa seis

en septiembre y que el deporte escolar se podría reanudar con normalidad con el comienzo del curso escolar siguiendo esa previsión a finales de agosto y ante la inminente apertura de las aulas los cargos responsables

a la temporada de deporte escolar en formato de entrenamiento y retrasar por cautela a enero el inicio de la competición

y se establecieron los protocolos precisos para abordar las diferentes situaciones que se pudieran plantear estas decisiones fueron adoptadas como le he dicho el veinticuatro de agosto

con el inicio del curso escolar el siete de septiembre los departamentos de sanidad y educación publicaron un documento titulado

veintiuno siete de septiembre tasa

tras la incorporación del alumnado a los centros escolares el dos de octubre tasa

se aprueba el protocolo complementario de actuación para el curso por el que se autorizaron las actividades extraescolares incluidas las de deporte escolar veintidos de octubre tasa cuatrocientos dieciocho

en grupos o subgrupos de seis personas y se mantiene la suspensión de las competiciones seis de noviembre tasa setecientos setenta y ocho

doce de enero tasa trescientos veintiséis otro decreto de lehendakari establece que se podrán reanudar los

en grupos de hasta seis personas siempre las mismas

quedando suspendidos en aquellos en los que se encuentren por encima de quinientos veintidos de enero tasa quinientos siete otro decreto del lehendakari mantiene

diecisiete de febrero tasa cuatrocientos cuatro la comisión de cultura euskera y deporte de este parlamento aprueba con la abstención de su grupo el siguiente texto el parlamento insta al gobierno a que en colaboración con diputaciones ayuntamientos clubes y federaciones tome la iniciativa de poner en marcha el deporte escolar en burbujas y espacios abiertos en los centros escolares a partir de enero cumpliendo en todo caso los requisitos exigidos por la situación epidemiológica y elaborando los criterios a cumplir con los clubes hoy

siendo la última tasa conocida doscientos veinticinco se reunirá el labi y se adoptarán las decisiones correspondientes a la espera de la reunión de los

estos han propuesto que se permitan los entrenamientos y se mantenga suspendida la competición del deporte escolar en esta delicada situación sanitaria que hemos vivido desde el inicio del curso escolar y deportivo las instituciones vascas han hecho todo lo posible para que las personas en edad escolar

de la educación general presencial en condiciones de seguridad y salud ha sido una prioridad algo que hasta el momento se ha conseguido de forma razonable y sin ningún tipo de interrupción asimismo desde que finalizó el confinamiento domiciliario en junio

para que las personas en edad escolar pudieran practicar la actividad física

señor barrio es propósito del gobierno hacer todo lo posible para evitar el confinamiento domiciliario general

recibir la educación presencial y siempre que sea posible mantener los entrenamientos organizados de deporte escolar desconocemos la situación sanitaria a la que nos enfrentaremos los próximos meses

ha fijado cinco escenarios en función de los cuales se irán adoptando las medidas previstas para cada uno de ellos

y de acuerdo con los responsables forales y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que en escenarios

se pueda cumplir la petición aprobada por la comisión de cultura euskera y deporte eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

en relación con el deporte escolar y su situación bien y

de la iniciativa aprobada echábamos de menos

ya se están haciendo planteamientos y digo los colectivos que se dedican a estas cuestiones de la misma manera que hacían planteamientos los autónomos u otros colectivos profesionales en relación con sus restricciones o sus imposibilidades

de planteamientos además de competición limitada de la temporada es decir

normal no puede haber temporadas o ligas normales sino que tiene que haber un planteamiento ad hoc no y entonces sí que nos gustaría saber también por dar referencia a quienes planifican

sí está descartada por parte de las autoridades igual ya la competición en el deporte escolar antes del verano no está bien claro que esto va por cursos escolares y ya pues nos estamos acercando al final pero sí que saber si está descartada sus efectos de planificación en relación con este tema ya sabemos que además eso responde

el plan bizi berri cuando dice que en tendencia a la baja donde estamos no valorar la competición es decir son escenarios en los que yo le pregunto son escenarios del propio plan

esos escenarios se pueden además adecuar a lo que es la dirección de deportes de su departamento en unión con

harán las diputaciones que también serán podrán ser consultadas o llamadas por

sí que saber si está descartada la competición vuelvo a decir en el ámbito de la organización y de las posibilidades de organización todavía

de competición pero se tienen que articular y que se tienen que organizar y modular y por eso mismo ese es el interés de saber si la competición

porque sí nosotros entendemos que bizi berri cumpliendo los criterios

con el tema del descenso la tendencia a la baja que todos hemos comentado además con las vacunaciones que cada día son más importantes y

estamos en ese plan que el propio gobierno vasco y el propio plan

que hay que dar un paso más en lo relativo al deporte escolar

al entrenamiento ya se han dado pasos todavía quedan algunos por dar porque están limitados en determinadas disciplinas deportivas pero sí en la competición

es muy importante que el deporte escolar es decir y la competición estén ahí son la competición

vemos que en el deporte profesional en el deporte semiprofesional lógicamente en otras cualidades pero también en el deporte federado de gente joven

se puede dar un paso más desde luego siempre en las claves de lo que marca

la fase de deporte escolar que sale en el plan bizi berri y las fases
que responden a la situación de la pandemia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna